egun on legebiltzarkideok hoy traemos desde nuestra coalición elkarrekin podemos

que finalmente ha sido transaccionada con el grupo eh bildu les entregarán la transacción enseguida

según hemos conocido también el respaldo del partido socialista que desde un primer momento también nos comunicó que estaba de acuerdo con lo que se proponía traemos básicamente

una moción declarativa sobre los efectos que los próximos presupuesto generales van a tener sobre los y las pensionistas sobre las pensiones públicas

miles de personas en nuestras calles esta misma semana las asociaciones de pensionistas y jubilados salían una vez más a manifestarse y dijeron claramente el pasado lunes que la actualización de las pensiones propuestas por el gobierno y que

es a todas luces insuficiente los pensionistas lo han dicho claro que no se apoyen

de las pensiones se trata de una iniciativa por tanto que busca un posicionamiento de claro rechazo por parte del parlamento vasco

para las clases populares de nuestra sociedad van a permitir la consolidación de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas un año más y lo hacemos porque a nosotros nos parece importante dar respuesta desde este parlamento al clamor popular que hay en este momento en las calles

por esa razón ya trajimos la iniciativa que fue aprobada el pasado uno de marzo sobre medidas concretas que pensamos oportunas para defender y mejorar el sistema público de pensiones

va a ser ignorada nuevamente si se aprueban los presupuestos generales que ha planteado el gobierno de mariano rajoy el pasado uno de marzo

el resto manifestamos nuestra posición favorable a que las subidas de las pensiones se tiene que hacer vinculada al ipc para evitar que estas sigan perdiendo poder adquisitivo aquel día y en debates posteriores sobre pensiones en este parlamento nos emplazamos a que aquella pnl no se quedase en una mera declaración de intenciones

entre ellas la de la subida de las pensiones con arreglo al ipc en estos momentos ya sabemos que si se aprueban esos presupuestos generales del estado

de las pensionistas y se consolida la pérdida de poder adquisitivo general de las pensiones públicas los presupuestos generales del estado son los que van a ejecutar

en nuestra opinión por eso pensamos que este parlamento debe expresarse en el mismo sentido que se están expresando las y los pensionistas de euskadi y criticar el efecto nocivo que sobre la calidad de vida de nuestros mayores van a suponer los presupuestos generales del estado dos mil dieciocho y en consecuencia rechazarlos abiertamente expresando el sentir mayoritario en nuestra opinión de la sociedad vasca aquí en esta cámara

aprobados por el partido popular y el partido nacionalista vasco entre otros partidos supusieron una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos de política económica

del mismo dos elementos claves para la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones españa de la mano del gobierno del partido popular ha sido durante los últimos años la campeona del ajuste presupuestario de la unión europea y también del ajuste fiscal algo que no fue una excepción en los presupuestos de dos mil diecisiete y que sigue la misma senda en los de dos mil dieciocho que aún no han sido aprobados por falta de apoyos hasta el momento al partido popular

y desmantelar lo público incluidas las pensiones públicas con los presupuestos para el dos mil dieciocho el gobierno

con su apoyo a que se afiancen las consecuencias de las políticas del partido popular de los últimos años incluidas las que afectan a las pensiones públicas

hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad pobreza y exclusión social en el marco de la unión europea españa es uno de los países de la unión europea donde la desigualdad

y no deja de crecer hoy como saben ustedes tener un trabajo en españa ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza

y esto afecta de manera potente a los recursos que debemos destinar a nuestras pensiones públicas puesto que las bajas cotizaciones por salarios de miseria no permiten al sistema de pensiones disponer de los recursos que debería tener

la erosión del llamado estado del bienestar derivada de las políticas de recortes en los presupuestos generales de los últimos años

esta situación españa de acuerdo a los datos más recientes mantiene un déficit estructural con la eurozona en protección social cercano al cinco por ciento

es una de las partes fundamentales del sistema de protección social que se están viendo afectadas negativamente por las reformas realizadas

se ejercita en parte a través de los presupuestos generales del estado

la subida vinculada al ipc en vez de reducir las desigualdades erradicar la pobreza y la exclusión social los presupuestos generales para el dos mil dieciocho al igual que los del dos mil diecisiete se empeñan en reducir el déficit público a costa de aumentar el déficit social otro año más

antisociales a los que ya nos tiene acostumbrados el partido popular el año pasado su aprobación solo fue posible gracias al apoyo del partido nacionalista vasco

algo que habían venido negando que pasaría de manera especial durante la campaña electoral ahí está la hemeroteca para comprobarlo pues bien

no solo acabó entendiéndose con el partido popular sino que acabó siendo la respiración asistida que tanto necesitaba el ejecutivo de mariano rajoy para resistir en un momento en que sin mayoría suficiente y asolado por la corrupción brutal de su partido no hubiera podido resistir mucho más

estamos en una situación con algunas similitudes el partido nacionalista vasco de momento dice que de apoyar los presupuestos generales del partido popular en estos momentos nada de nada al menos mientras siga aplicándose el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución

es una buena noticia pero ante lo que nos preguntamos qué va a hacer el pnv una vez deje de aplicarse el artículo ciento cincuenta y cinco sobre el autogobierno catalán

es la única razón por la que se deben rechazar los presupuestos del partido popular para nuestro grupo la respuesta es clara no es la única razón desde luego a nosotros y creemos que a la mayoría de la sociedad vasca no nos parece la única razón

del partido popular nos parecen razón suficiente para seguir diciendo no a los presupuestos generales del partido popular a nuestro grupo

despropósito pero acaso la ausencia de la aplicación de ese artículo hace que los presupuestos generales del partido popular sean mejores y puedan ser apoyados los presupuestos generales presentados para el dos mil dieciocho continúan las políticas de austeridad emanadas de los lobbies del capital y que tanto daño están haciendo a los derechos sociales

es decir consolidan la pérdida de poder adquisitivo de las mismas por el contrario una de las políticas de gasto que se incrementa de nuevo por segundo año de manera más que significativa es el gasto en defensa

que incrementa en seis coma nueve por ciento respecto al año

no hay dinero para incrementar las pensiones a la par que sube el ipc el coste de la vida pero sí hay dinero para aumentar el presupuesto de tanques misiles y fragatas en prácticamente un siete por ciento que alguien le explique esto a los pensionistas

un siete por ciento asimismo el gobierno ha elaborado unos presupuestos que no sirven para aumentar los ingresos del sistema público de pensiones las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son dramáticas y apoyar esos presupuestos esas posiciones no es de extrañar que hayamos conocido esta semana a través del cis que aumente de manera notable la preocupación por la situación de las pensiones

la segunda preocupación sigue siendo la corrupción cada día vemos el desfile de corrupción latrocinio y saqueo de las arcas públicas que se produce por parte de corruptores y corruptos y quienes han diseñado estos presupuestos pertenecen precisamente ya lo hemos dicho en otras

estructural y envuelto en cientos de casos de corrupción y quienes lo respalden en nuestra opinión están en estos momentos respaldando también ese modelo debemos rechazar desde el parlamento vasco unos presupuestos al servicio de las élites

si hay dinero para tanques debe haberlo para actualizar las pensiones de manera acorde con la subida del coste de la vida las y los pensionistas de euskadi lo tienen claro

hagamos que este parlamento se convierta hoy en expresión de esa reclamación mayoritaria en nuestra sociedad asegurémonos en este parlamento que en euskadi nadie diga que va a pactar unos presupuestos en nombre de los intereses de la ciudadanía vasca

en contra de la opinión mayoritaria de esa misma ciudadanía expresada en las calles asegurémonos de que nadie utilice la dignidad de nuestros mayores como moneda de cambio

nosotros tenemos claro que la opinión de este parlamento mayoritaria coincide con la opinión de la calle los presupuestos generales presentados por el partido popular perjudica a la mayoría de la sociedad y de manera concreta perjudican a las y los pensionistas

que este parlamento se exprese en esta dirección y nos exija a los partidos que formamos parte de esta cámara y que firmamos o votamos

una iniciativa con medidas concretas sobre las pensiones que cumplamos con aquel compromiso hasta sus últimas consecuencias negociar o respaldar unos presupuestos generales del estado

la reclamación de actualizar las pensiones con arreglo al ipc es traicionar aquel acuerdo que alcanzamos en esta cámara eskerrik asko

con tanto españa españa españa cuál es su verdadero objetivo con esta iniciativa si a usted le preocupa efectivamente la situación de los pensionistas y las pensionistas en euskadi o lo que le preocupa de verdad es situar este debate político y posicionarse en un debate que debe darse en otro foro e ir preparándose ya para aquel foro

sabe cómo se le llama a eso utilizar y mezclar torticeramente

el de las pensiones y el de los presupuestos generales del estado y sabe lo qué es eso utilizar a las pensionistas y a los pensionistas de euskadi para su interés propio para su interés propio eso es lo que está haciendo usted y ustedes podemos eso es lo que están haciendo

pierden oportunidades políticas pierden oportunidades de avanzar desde el acuerdo y desde el consenso en política y eso es una pequeña tragedia en política

utilizando porque aquí el debate de las pensiones como usted ha dicho ya se realizó se ha realizado en marzo el uno de marzo el acuerdo de uno de marzo le comentaba antes al señor egibar es como

porque tiene una relevancia importante porque es un acuerdo muy completo

donde podemos ir avanzando porque tiene un amplio consenso político logrado en esta cámara y ustedes lo vuelven a traer porque a diferencia de lo que por ejemplo los sindicatos ayer leía en la prensa decía euskadi la única

y dicen no queremos ningún tipo de protagonismo queremos preservar la unidad que está

donde el protagonismo corresponde a la sociedad y ustedes no están preservando la unidad que se logró y solo por su propio interés

diciendo que ratificamos lo que se acordó el uno de marzo guk beti aldarrikatu izan dugu guk gura dugula kudeatu gizarte segurantzaren

si nosotros ratificamos por eso presentamos nuestra enmienda

porque ratificamos lo de aquel acuerdo y además el veintidós de marzo también se hizo otro debate en relación con las pensiones

realmente le preocupara la situación de las y los pensionistas en euskadi lo que aquí en euskadi se está haciendo mientras tanto y cómo estamos en una situación y estamos en una situación de privilegio

y mejorar en la medida de lo posible y partiendo siempre del principio de realidad cómo aquí la situación es desde nuestro ámbito competencial mejor

la prestación complementaria de vivienda porque se les ayuda desde las ayudas de emergencia social porque se les ayuda a financiar las medicinas eta zuek y ustedes podemos lo que tendrían que hacer es en vez de estar pensando continuamente en el oportunismo político y en situar su debate en madrid

ponerse las pilas porque ya tienen qué hacer porque ustedes gobiernan en muchos sitios

por el modelo de protección social de euskadi para ver lo que se hacía aplaudía lo que se hacía aquí pues copien pónganse las pilas ustedes allí donde gobiernan

porque volviendo a lo que usted mezcla yendo a lo que usted mezcla y a lo que usted le preocupa que son los presupuestos de madrid

es que se aprobaron con los votos del pnv qué hicieron ustedes qué hicieron ustedes cuando se nombró

oportunismo político ustedes no toman decisiones ustedes solo hacen discurso porque si realmente quisieran otras mayorías

hacer viables y no las hacen ustedes ustedes hacen discurso y nada más qué hubiera pasado el dos mil diecisiete si no se hubieran aprobado los presupuestos

cuál hubiera sido la situación cuánto se les hubiera incrementado la pensión cero coma veinticinco verdad es utilizar torticeramente porque no es cierto

se establece en los presupuestos se establece en la ley veintitrés barra dos mil trece como usted y si los presupuestos hubieran ido a prórroga en qué situación estarían señor hernández en la misma y ustedes engañan para provecho propio a la sociedad vasca pretenden engañar pero no engañan

decía el pnv para beneficiar oiga mire el pnv siempre ha dicho y lo dice en campaña electoral y lo dice en todos los sitios que va a madrid no con voluntad de gobernar como usted

sino con ánimo de defender la agenda vasca que tiene distintos ámbitos ámbitos sociales ámbitos económicos ámbitos de derechos humanos y nosotros vamos allí a defender y eso es lo que miramos en los presupuestos nosotros no nos preocupamos de todo el presupuesto del modelo de protección social nos gustaría que fuera como el nuestro cómo no

nosotros tenemos una máxima defender nuestra agenda vasca en beneficio de la sociedad vasca y siempre sin perjudicar a nadie beneficiamos al máximo de gente que consideramos pero sin perjudicar y decir que el cero coma veinticinco es con el presupuesto donde se establece es

no tiene otro nombre mentir porque si se va a prórroga presupuestaria

una salida viable lo han hecho una alternativa lo han hecho

pues ya veremos y le voy a pedir el presupuesto del dos mil dieciocho

sin ciento cincuenta y cinco son mejores los presupuestos bueno bien a ver

del partido nacionalista vasco así lo han dicho mientras esté vigente nosotros no entramos a negociar los presupuestos es una condición como se diría en matemáticas suficiente necesaria pero no suficiente pero se tiene que dar necesariamente pero usted señor martínez su compañero

su partido dijo a cuenta de si en el ciento cincuenta y cinco son mejores los presupuestos pues usted sabe lo que dijo

son presupuestos hechos pensando en euskadi y claro

son presupuestos hechos pensando en euskadi pues si usted dice que son presupuestos hechos pensando en euskadi parece que coincide con el partido popular nosotros tenemos claro cuál es nuestra condición nuestra condición sine qua non

nuestra condición necesaria para que podamos seguir avanzando y luego tenemos otros ámbitos para poder negociar pero desde luego

están cerrando la posibilidad a seguir trabajando

hautu politiko baten ondoriozko aurrekontu eredua da miren el modelo presupuestario que está en vigor en el estado español nosotros lo poníamos en nuestra enmienda de una manera bastante sencilla y bastante inteligible

es un modelo basado en una austeridad extrema yo diría en una austeridad mal muy mal entendida

de pepe múgica diciendo que la austeridad se había prostituido en europa y tiene toda la razón porque la austeridad es otra cosa pero

en el estado español son los presupuestos y una política presupuestaria un modelo presupuestario basado en el ataque frontal al estado de bienestar son unos presupuestos

son un modelo presupuestario basado en llevar el sector público las políticas públicas a su mínima expresión eso es lo que está en la base del modelo presupuestario vigor en el estado español y ese es el problema no un presupuesto del diecisiete o un presupuesto del dieciocho esto viene de atrás bastante de atrás y tiene muchas cosas en sus bases

ese modelo presupuestario también nos toca aquí en la comunidad autónoma vasca de cierta

es una ley que aquí normalmente más de uno y más de dos se les intenta quitar de encima yo no hice

pero claro luego llegan los límites de gasto y se aprueban luego llegan los límites de déficit impuestos por el señor montoro

y así es como hacemos algunos hacen algunos política presupuestaria luego cuando llegan los pensionistas décimos que sí salimos con ellos en la pancarta décimos que les apoyamos en todas sus reivindicaciones pero cuando hay que hacer donde dije digo

es verdad que no fueron a las movilizaciones de los pensionistas pero evidentemente algún grito le llego a la moncloa llegaron a la moncloa y ha decidido hacer presupuestos generales

pura y llanamente electoralistas respecto a los pensionistas respecto a los funcionarios y funcionarias del estado o respecto a los policías guardias civiles etcétera entre otros colectivos es decir

que solo se han preocupado de poner parches en aquellas cuestiones que aparentemente podían tener un efecto electoral

la política española y digo parches claro porque solo se han preocupado de alardear que creen que a lo mejor consiguen silenciar a nuestros mayores en sus reivindicaciones pero de que el sistema se pueda hacer sostenible de darle largo plazo ya de eso como diría aquel famoso presidente ya veremos

es decir nos preocupamos de hacer unas medidas unas pildoritas

de color rojo que queden bonitas pero por otro lado claro

con otras fuerzas y entonces los ingresos en vez de

los hacemos más bajos porque como aparentemente todo va bien en la economía española esa economía española donde los pensionistas que cobran menos del salario

son más de cinco millónes donde el paro juvenil es uno de los más altos de europa y es absolutamente vergonzoso

se está creando empleo porque se están reduciendo las prestaciones de desempleo claro voluntariamente se olvida uno de que hay tantos desempleados de larga duración

a recibir prestaciones por desempleo pero eso es también ya tal como decía aquel famoso

del mundo mundial y del no sé del mejor país del mundo porque algunos titulares de prensa sinceramente eran

alucinantes también hemos escuchado a algún mandatario del partido popular

son las señoras y los señores de esta bancada no pero sí sus compañeros de filas en madrid o

el euzkadi buru batzar o como sea que ustedes negocian esas

de la intervención y les ponen sobre la mesa esas inversiones en el tren

si fuera por todos los empleos que se generan en este país por cada presupuesto que firman algunos yo no sé por qué los jóvenes no tienen trabajo en este país no lo entiendo porque entre tres siete mil tres mil a mí no me dan lo números sinceramente no me dan los números son los presupuestos otra vez insisten en que pensionistas viudas

muy por encima incluso de las partidas de pensiones por lo tanto

cuestión de modelo es una cuestión de modelo un modelo que no mira

y de una ideología muy concreta que tiene muy claro que cuanto más pequeño sea el sector público más pequeño sea el estado propiamente dicho

mejor para ellos porque estos presupuestos del estado tienen un gasto público inferior

incluso que el año dos mil siete incluso que el año dos mil siete contempla unos ingresos record que nadie sabe muy bien de dónde van a salir incluso los propios empleados trabajadores de la agencia tributaria no acaban de creérselo la onu les dice que por favor se empiecen a poner las pilas

mal entendida como he dicho previamente pero es que insisto todas estas medidas y esta política presupuestaria y esta política de reducción de las pensiones y de dejar a todos nuestros pensionistas en una situación más cercana a la pobreza que una vida digna no es una cuestión de consecuencias de la crisis

es una cuestión de decisión política de modelo de país de modelo presupuestario

y ustedes lo que quieren para el futuro del país es esto porque ahora se les llena la boca hablando de pensionistas y de sueldos de funcionarios

la reforma laboral que ustedes hicieron que ha hecho que los trabajadores pobres sean una realidad en el estado y también en nuestra comunidad autónoma se les olvidan los recortes en sanidad los recortes en educación y todas

azkenengo esaldia presidente andrea eskertuko nizuke y todo eso está encima de la mesa no es solo el ciento cincuenta y cinco hay mucho más en estos presupuestos

tengo que reconocer que la señora pinedo sí que me ha sorprendido pero a los miembros de la mesa que en un mes tengamos tres debates sobre pensiones

esto de que no se podían repetir temas en el mismo periodo de sesiones

cuando menos curioso el señor hernández nos dice que cada vez hay más gente preocupada por las pensiones y tiene razón porque hay grupos como el suyo

porque saben que a ustedes las pensiones y los pensionistas les importan un comino sí sí

pero fíjese lo contradictorio del discurso de la señora pinedo con el suyo

son electoralistas porque tienen medidas a favor de los pensionistas y usted nos dice que no que es en contra y van a votar lo mismo y entonces uno dice bueno vamos a ver aquí a qué hemos venido

que en fin su jefe de filas en madrid leerá cuando toque no sé si

en asturias en canarias y en navarra porque también hay grupos allí que apoyaron los presupuestos del gobierno de españa y también hacen falta sus votos entonces no sé si presentarán lo mismo allí aunque gobiernen ustedes para hablar de los pensionistas verdad porque el pnv sí aprobó los presupuestos el año pasado pero también hubo navarros

van a hacer lo mismo o se les va a olvidar o se les va a olvidar porque este es el fin de esta

lo que usted nos ha traído nos dice primer punto

en fin que los vascos salían muy beneficiados pero era malo para el resto de los españoles

y el segundo punto nos dicen que tiene que garantizarse que las pensiones se actualicen en los presupuestos conforme al ipc oiga el doble que el ipc previsto

cuando el ipc previsto no llega ni al uno y medio ni al uno y medio llega

del tres por ciento le molesta le molesta porque le gustaría que bajaran el tres por ciento

y para actuar en contra de los intereses de los pensionistas y de las pensionistas vascas y en contra de los intereses de todo el mundo

preocupada por sus pensiones porque saben que si alguna vez gobernaran ustedes

y dejarían de cobrarlo y claro que cada vez hay mayor preocupación no va a haber si solo hace falta oírles si les da igual les da igual y aquellos señores van por el mismo camino pero ellos sabrán se suponía que eran un partido de gobierno

sí pero del ajuste bien entendido y en todo

el único sector de la población que no ha perdido poder adquisitivo han sido los pensionistas el único también le molesta

sí sí hombre es electoralista y es un guiño claro es un guiño

en este parlamento hemos aprobado algunos

un punto y medio pero todos sabemos que si no hay presupuestos en el dieciocho y se prorroga el diecisiete la subida es del uno por ciento por lo tanto

presupuestos del estado del dieciocho se oponen a que a los funcionarios vascos se les suba el sueldo el uno coma cinco por ciento

eso es actuar en beneficio de los funcionarios vascos en este caso

los presupuestos del estado se prevé una subida incluso mayor del uno coma siete por ciento

y usted no nos ha dado ningún argumento de las pensiones ninguno se ha hecho el discurso también la señora pinedo el discurso a los presupuestos los ricos tal no sé qué los sectores no sé cuántos manejan mangonean tal en perjuicio de la gente en perjuicio de la gente actúan ustedes claro me decían no es que

vamos a ver mire son unos presupuestos probablemente a usted le molestará mucho pero se lo tengo que decir que cumplen los acuerdos firmados con los sindicatos

subida máxima en tres años del ocho por ciento a usted le molestará porque supongo que es anti sindicalista cumple con eso esos presupuestos que usted viene aquí a oponerse y que se opondrá en madrid

cumple con el pacto de estado que votamos todos los grupos creo que incluso el suyo y el suyo contra la violencia de género dotándolo con doscientos millónes de euros

también cumple con ese pacto que firmaron todos ustedes y eso va en esos presupuestos y evidentemente cumple con el pacto con las demás comunidades autónomas

con los pactos del año pasado que se prorrogan y que tienen que tener su continuidad en el presupuesto del dieciocho y que evidentemente nos afectan a los vascos vaya si nos afectan claro que nos afectan no sé si está en la agenda vasca

o la supresión de los pasos a nivel ustedes aquí hablaban no hace mucho no hace tanto

a nivel en zorroza en estos sitios pero ustedes votan en contra

de las cosas que afectan a la gente porque hacen su discurso

pero es evidente que en esos presupuestos hay inversiones en el país vasco

no sé si el gobierno vasco va a invertir mil millónes de euros este año en el país vasco el gobierno de españa

la inversión no genera empleo lo destruye

pues nosotros tendremos que decirles que en fin que son unos presupuestos

pero en fin nunca hemos visto unos presupuestos del estado que beneficien individualmente a tantos vascos claro pensionistas

vascos ya lo siento lo digo por usted estaría encantado que saldrían perjudicados más todavía no sesenta y seis mil

afectados por la subida del tres por ciento claro las pensiones de viudedad que sube la base reguladora del cincuenta y dos al cincuenta y cuatro y se prevé que el año siguiente pase hasta el sesenta

doscientos cincuenta euros al año la pensión ya sé que a usted le molesta lo siento mucho mientras usted está para perjudicar a la gente nosotros estamos para resolver los problemas de la gente dentro de nuestras limitaciones y sabiendo cuáles son los ingresos

fíjese usted que allí tienen una cierta ventaja digo los pensionistas del resto de españa porque como aquí tenemos la competencia fiscal

se rebaja el irpf especialmente a los pensionistas con rentas inferiores a dieciocho mil euros y la exención en el irpf hasta los catorce mil euros por lo tanto

pero esto es lo que viene en los presupuestos del estado que usted ha salido a criticar y se le ha olvidado contarnos

una película y a los funcionarios que también es electoralista según la señora pinedo

es lo que pide la gente eso es ser electoralista

lo que pide la gente entonces estos presupuestos recogen lo que pide la gente

y con pensionistas no con los que salen a la calle que les da igual cualquier cosa

que sea otra cosa nosotros somos un partido serio señor hernández

y lo vamos a seguir siendo y además vamos a intentar que cada vez cobren

bien al grupo socialista le parece muy bien y quiere agradecer que el debate sobre las pensiones

como ya dijimos en la última ocasión que tuvimos en el último pleno que celebramos se trataba de verdad era lo sustantivo consolidar un sistema público que garantice la suficiencia de ingresos en los hogares de las personas jubiladas o como dice literalmente el artículo cincuenta de la constitución como bien nos lo recuerdan todos los lunes en las calles los pensionistas

y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad porque

había un riesgo de desviar el debate hacia los complementos y eso solo sirve

quien lo sigue escurriendo con propuestas cicateras o chantajistas

y para el futuro el que propone a un colectivo pensionista empobrecido tras negar la mayor

que su mejora tiene que quedar condicionada al futuro político personal

el que propone a una clase trabajadora empobrecida a la que desvistió de protección con la reforma laboral que ahorre de unos salarios que no cubren ni los gastos más elementales

el futuro del sistema público de las pensiones en españa no depende del futuro de los presupuestos generales del estado que ustedes han presentado ni tampoco del futuro del señor rajoy el futuro del sistema público de pensiones depende de la derogación de la ley del dos mil trece que ustedes aprobaron con su mayoría absoluta y abusando con prepotencia del ejecutivo del que siguen presidiendo depende de derogar la desactualización de los incrementos en un cero coma veinticinco y su vinculación al ipc que es lo que establecía la ley que sí había sido acordada entre diferentes partidos en la anterior etapa depende de que se derogue el factor de sostenibilidad inventado por ustedes para cargarse el sistema público y favorecer un sistema privado de ahorro para favorecer un sistema dual de jubilación

con posibles pueda pagárselo y una mayoría de pensionistas sigan siendo pobres depende también de que el gobierno abandone su arrogancia y asuma la urgencia de buscar un nuevo acuerdo que pase por otras fuentes añadidas de sostenibilidad de ingresos como la eliminación de todos los gastos de la seguridad social que no sean estrictamente prestaciones

de ingresos analizando también las figuras impositivas y nos parece que ya basta de chantajes si se admiten esos criterios que compartimos mayoritariamente en esta cámara y que se comparten también de forma mayoritaria y plural en el congreso de los diputados estaremos atendiendo esa demanda de los nueve millónes de pensionistas en españa medio millón

es verdad es una subida del tres por ciento durante cuánto tiempo para este año

la normativa del dos mil trece al año siguiente estaremos en la misma situación

y al siguiente y dependerá de la gracia que ustedes quieran hacer o no en función de sus intereses políticos concretos para que se mitigue el daño que las manifestaciones de pensionistas entienden ustedes

electorales y ese es el motivo de que ustedes recojan esos incrementos pero que son pan para hoy y hambre para mañana si no se modifica la ley que recoge que el procedimiento de incremento pues el año

de la que yo me alegraría para las pensiones mínimas y al siguiente y en los años venideros

dependerá de si siguen teniendo el talón apretado porque les están comiendo la tostada desde el otro partido de la derecha de este país y quieren quitarse de encima ese riesgo por eso décimos que esto la solución de las pensiones no pasa por aprobar los presupuestos de ese año pasa por derogar

por derogar la reforma laboral que desprotege a los trabajadores y por recordar algo que tiene muy olvidado este gobierno pero la verdad es que tenemos dudas de que se vaya a hacer así tenemos dudas porque el señor rajoy desde que entró a la moncloa ya tenía un plan

que se han venido sustentando en la sanidad pública en la educación pública y en las pensiones públicas todos ellos decreciendo en los últimos años y con problemas serios y han aparecido mareas de todas clases tanto en tema educativo

como el de ahora los pensionistas no todo el mundo va a estar equivocado y ustedes son los únicos que tienen razón esa es la percepción ciudadana

el eufemismo del factor de sostenibilidad esas son las marcas que dejará

de derechos y libertades y la impasibilidad y la inacción

por eso nosotros vamos a respaldar la propuesta que hoy se nos trae aquí porque compartimos que los presupuestos actuales han empobrecido a una parte sustancial de la ciudadanía

los ingresos de los mayores y porque es falso que el fortalecimiento del sistema público pase por aprobar estas cuentas eso ya son engaños que créame usted no se creen ninguno de los pensionistas que salen a la calle o que no salen pero están también cabreados con ustedes

supimos liderar desde los primeros gobiernos de la democracia en medio de duras crisis como las que padecemos en euskadi la consolidación de un sistema público de pensiones

a quienes por distintas razones ni siquiera habían podido contribuir supimos liderar entre el dos mil cuatro y el dos mil once los acuerdos que incrementaron las pensiones mínimas

oficiales no del partido socialista de un cincuenta por ciento de incremento el doble del aumento de la inflación y hasta un sesenta y seis por ciento para el caso de la viudedad

y dejamos abierto el foro del acuerdo para afrontar nuevas medidas ante la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom ese es todo el caudal dilapidado por ustedes y esa es la vía que hay que intentar recuperar

y no vamos a eludir la responsabilidad que tenemos aquí para atender a quienes se han descolgado por el camino

por ese artículo cincuenta de la constitución en la prestación de servicios sociales en la compensación por los repagos farmacéuticos en las ayudas para atender sus facturas en el derecho a la vivienda en los complementos de renta a través de la rgi y en este último queremos llegar a quienes

a esos abuelos y abuelas que han tenido que hacerse cargo de sus descendientes empobrecidos aunque trabajen de los nietos que han tenido que refugiarse en unas pensiones que no estaban pensadas para estas atenciones sobrevenidas para ayudarlos a pesar del trance no para crear un sistema paralelo que salve al gobierno de españa de su responsabilidad

en un sistema que es solidario entre generaciones y entre territorios por eso con esta misma claridad con la que los socialistas vamos a respaldar hoy

para que participen en los acuerdos para mejorar el sistema de protección social en lo que aquí nos compete lo mismo que la propuesta de hoy no sirve por sí misma para garantizar las pensiones

la reforma de la rgi no saciará todas las aspiraciones que tengamos

a muchas familias a las que ahora no llegamos muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

sí nos pide la señora gorospe que
le aclaremos cuáles son los objetivos de nuestra iniciativa yo creo

no tengo ningún inconveniente en volver a explicarle cuáles son los objetivos

de nuestra iniciativa lo he dicho en mi anterior intervención en primer lugar

que es la cámara representativa de euskadi de nuestra comunidad autónoma en estos momentos exprese claramente una opinión que nosotros pensamos que es absolutamente mayoritaria en las calles y que está siendo así

de manifestaciones una opinión que se basa entre otras cosas la iniciativa de hoy

que perjudican entendemos nosotros y así entienden también porque lo están diciendo esta semana en las calles

a la situación de los pensionistas a los de euskadi y a los del conjunto del estado porque a mi grupo nos preocupa la situación

en las que a veces nos ponemos de acuerdo con ustedes y otras muchas veces no pero que traemos a este parlamento y nos preocupa también

del resto del estado y además nos sentimos orgullosos de este planteamiento

en lo concreto de aquel acuerdo alcanzado el uno de marzo en lo concreto porque todos los grupos que votamos a favor décimos que nos mantenemos en aquel acuerdo pero es que la primera prueba de fuego de aquel acuerdo viene con estos presupuestos generales del estado

del estado sí que ejecutan yo he hablado de que ejecutan esa pérdida de poder adquisitivo en este año dos mil dieciocho los ejecutan y por lo tanto nos parece y esto es lo que venimos a decir con la iniciativa que respaldar esos presupuestos generales

traicionar uno de los contenidos de aquel acuerdo que alcanzamos el uno de marzo que es la defensa de una subida de las pensiones en este momento con arreglo al ipc para el conjunto de las pensionistas a nosotros nos preocupan nos pregunta usted si nos preocupan los pensionistas de euskadi o si nos preocupan los presupuestos generales de madrid como usted ha dicho los presupuestos generales no son de madrid

y nos afectan a todas y a todos los que vivimos en el estado español nos guste más o menos pertenecer al estado español o pertenecer como es mi caso

y por lo tanto nosotros cuando nos preocupamos de los pensionistas de euskadi y nos preocupamos de los presupuestos generales del estado entendemos que nos estamos preocupando de una misma cosa

y por eso pensábamos que es importante que este parlamento se manifieste en ese sentido y a mí me parece que también es un ejercicio de autogobierno que el parlamento vasco

en otras instituciones nos afectan al conjunto de la sociedad vasca y hoy he escuchado

una coincidencia que a mí me parece preocupante entre el señor damborenea y usted señora gorospe

de qué pasa si los presupuestos generales en este caso del estado pero podría pasar con otro tipo de presupuestos hasta los de un ayuntamiento qué pasa cuando no se aprueban

unos presupuestos generales se prorrogan y todo es mucho peor según ustedes y por lo tanto nadie ningún partido político ninguna coalición ningún grupo

eso es lo que he escuchado hoy aquí hombre claro

ese argumento nos parece un argumento chantaje y nos preocupa escucharles que lo comparten con el partido popular

a quienes se manifiestan en las calles especialmente hoy por el señor damborenea una vez más

que sale porque sí a pedir más y más y si se concede que las pensiones se actualicen acorde al ipc pues entonces pedirán

a la gente que honradamente sale a manifestarse a las calles

y finalmente decirles también señora gorospe ustedes dicen hablan de la agenda vasca mucho y usted ha dicho hoy aquí que van a madrid a preocuparse de lo de euskadi y que lo demás bueno sin perjudicar pero como que no les importa bueno en primer lugar decirle porque para mí es importante a nosotros sí nos importa a nosotros sí nos importa

sí nos importa pero es que además esos presupuestos nos afectan como le decía y en el concreto en lo que hablamos hoy las pensiones la aprobación de esos presupuestos afectan a las y los pensionistas vascos los presupuestos generales del estado son también
agenda vasca nos guste más o nos guste menos eskerrik asko hernández jauna

esatea berbea berbea da eta tratuak horretarako egiten dira errepikatzeko es verdad es verdad señor hernández los presupuestos generales no son de madrid

yo no digo que quienes han estado en el congreso no les preocupe

su ámbito de intervención no es su ámbito

nosotros vamos a madrid a defender la agenda vasca los intereses de euskadi y la sociedad vasca única y exclusivamente de las y de los vascos pero que no nos preocupe que

eso es tergiversar el discurso es tanto como decir ahora que les estoy viendo que al consejero erkoreka le importa un pepino lo que el departamento de arriola bueno pero él se preocupa del suyo que para eso le ha elegido el lehendakari

nos eligen con una tarea nos presentamos a las elecciones con un programa electoral y procuramos ser coherentes con eso y eso es lo que defendemos sin entretenernos con otras cosas centrándonos en lo que estamos eso es lo que he dicho no que no su objetivo evidentemente ya sé cuál es badakit zuena zein dan espainia espainia espainia behin eta berriro

porque la gente nos elige para hablar para dialogar para hacer política eligen para eso y lo primero que tendríamos que hacer con el debate de las pensiones en este momento

de los presupuestos generales del estado señor hernández lo primero que tendríamos que hacer porque como usted bien sabe como usted bien sabe el debate del sistema público de pensiones es un debate que exige

el acuerdo del uno de marzo efectivamente fue un buen acuerdo y fue por esa línea necesita un debate independiente

en su conjunto sereno alejado de este tipo de disputas porque no estamos aportando nada si cada vez que ustedes creen que horadar la imagen desgastar la imagen de un gobierno

para ir intentando poner a determinadas formaciones políticas o gobiernos en situaciones que a ustedes les pueden parecer contradictorias guk

ez pankartan burua erakusteko hagamos política en femenino tanto que ustedes les gusta no solo las mujeres

pues dejemos de competir y colaboremos para mejorar la situación de las y los

iruditu está claro que el partido popular en madrid siempre lo hace todo bien

señor damborenea ha habido una frase sinceramente que me ha parecido un poco hiriente

los y las pensionistas que salen a la calle y ha dejado caer que no saben muy bien para qué salen

preocupado de negociar con quien tenían que negociar hombre

creo que es una frase muy grave si realmente usted es eso lo que piensa de los y las pensionistas que cada lunes salen a las calles de nuestras ciudades aquí en nuestro país a pedir y a exigir dignidad y unas pensiones dignas porque quieren llevar una vida digna

gauza da jatorrizko mozioa espainiako klabean zegoela beraz si en la moción habla de los presupuestos generales del estado yo hablo de los presupuestos generales del estado es más le tengo que decir que me sorprende eta benetan iruditzen zait

nik badakit non egin behar den honen inguruan y ha hablado del modelo presupuestario y ha hablado es verdad de medidas electoralistas porque es lo que me parecen porque no tienen nada detrás no tienen un sustrato no se han preocupado vestirlas con ingresos no se han preocupado de trabajar por un sistema de futuro porque a la vez que presentan eso ya se ha preocupado el señor damborenea y no lo esperaba menos de usted de dejar aquí claro esa bajadita

y dejadita al choco al partido nacionalista vasco de que también lo tenga en cuenta

pensiones de miseria esa cosa que dicen ustedes que van hacer en el irpf ni les toca

porque es que no pagan irpf porque son tan miserables sus pensiones que ni tan siquiera tienen el honor de hacer una declaración de la renta

en primavera por lo tanto dejémonos de medidas que todos sabemos que su impacto es más bien nulo o insignificante begira lehenengo

beharrezkoa zela baina ez nahikoa eta gero ortuzar jaunataz hitz egin didazu escuché atentamente la entrevista del señor ortuzar el otro día cuando le preguntaban llegué a contar cuatro veces si iban a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del estado y muy hábilmente no dijo nada

aprobó el partido nacionalista vasco ustedes dicen que tienen la agenda vasca y se preocupan de no perjudicar al resto

límites de gasto y otras muchas cuestiones con aquellos partidos que se han dedicado

que han llevado a que haya trabajadores pobres en el estado español ustedes me hablan de que quieren unas pensiones dignas y todas esas cuestiones pero son ustedes los que respaldan al partido popular que es el que ha hecho que las pensiones desgraciadamente tienen que seguir cobrando los pensionistas vascos porque usted me hablaba a mí de que hablo mucho de españa pero la realidad es que como sigan ustedes donde están

hablando de españa y de lo que españa hace e influye a los vascos y a las vascas y evidentemente también a los pensionistas y las pensionistas y esto es una cuestión y el ciento cincuenta y cinco será una condición necesaria para ustedes pero el problema es que el ciento cincuenta y cinco y las consecuencias del ciento cincuenta y cinco
no desaparecen con la formación de gobierno en cataluña eskerrik asko pinedo anderea

zurea da hitza la verdad es que estoy sorprendido porque tanta unanimidad criticando los presupuestos generales del estado

de hacer electoralismo pero vamos a ver pero qué les pasa a ustedes los que están pidiendo el voto en contra de esos presupuestos

porque son mejorables un poco pero casi pero casi

pues si no se vota todos saben lo que ocurre que se prorrogan los del dos mil diecisiete sí señor hernández se prorrogan los del diecisiete esos que la subida de las pensiones cuánto era de zero koma hogeita bost

claro y señor pastor lo mismo para usted esto es chantaje no

depende de modificar el del diecisiete que es el uno pero ya lo sabe

chantaje es engañar a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que es

señor pastor decirnos que el problema es que el sistema tiene que volver a ir relacionado

las congelaron y el sistema qué decía que había que subir el ipc y y qué paso congelado fuera eliminado

es la que los medios venden y la que algunos políticos

que ha decrecido el sistema público de pensiones que no ha hecho más que aumentar hasta aquel año de la congelación del señor zapatero se incrementó el gasto en pensiones

si ya supone el cuarenta por ciento de todo el presupuesto del estado el cuarenta por ciento cómo que ha decrecido no hace más que crecer

del año pasado a este año en más de cinco mil millónes de euros

es lo que cuesta el sistema de la seguridad social hoy a todos los españoles señora pinedo qué nos viene de madrid se lo dije el otro día es que esto de repetir los debates pues tres mil millónes para que los pensionistas y las pensionistas vascos

eso es lo que viene de madrid y del resto de trabajadores españoles con sus aportaciones y de los presupuestos del estado

me decían los dos que

eso no es cierto pero usted estará conmigo que cuando los que los convocan

y cuando la subida superior al ipc en más del doble del ipc se cambia y ahora que hay que salir para ir en contra de los presupuestos del estado oiga cada uno podrá hacer lo que le dé le gana pero usted me entenderá a mí

porque si vamos cambiando la convocatoria en función de lo que interesa

a favor en contra o mediopensionista pero es evidente que alguien va cambiando las convocatorias

y para qué se sale y vamos a ver el pnv

los nacionalistas catalanes con la agenda vasca del pnv o con los acuerdos que se llegaron el año pasado

sí sé que esos mismos nacionalistas catalanes denunciaron en bruselas un acuerdo sobre la tarifa eléctrica que afecta especialmente a trabajadores y empresarios vascos

porqué hay que defender a los que van contra los acuerdos que benefician a los vascos

casi todo dicho pero alguna cosa no puedo dejar de decirle al señor damborenea en primer lugar vuelvo a repetirle entre el dos mil cuatro y el dos mil once

y es cierto como usted dice que en el dos mil once se congelaron solo las pensiones altas solo a partir de mil euros y el resto siguió subiendo

hacen un cierto chantaje es verdad porque ustedes vienen a decir o se aprueban los presupuestos de rajoy o las pensiones no suben

deroguen aquella reforma del dos mil trece eliminen el factor de sostenibilidad y después a lo mejor podemos empezar a hablar

son buenos o malos porque ustedes están ahora absolutamente

porque ustedes tienen un mercado electoral enorme o lo tenían entre los mayores de sesenta años y están viendo que se les puede ir y para que no se les escape o tapar la fuga

y el cebo es este año os subimos el tres por ciento este año

es que para el que viene a lo mejor no hay nada o a lo mejor hemos vuelto a poner en riesgo la viabilidad financiera del sistema eso se lo olvida decir en fin yo ya entiendo que ustedes tienen que poner donde se puedan enganchar a ver si conseguimos desmovilizar una parte de los funcionarios a otra parte de los cuerpos de seguridad a otra parte de los pensionistas y así minimizamos el daño pero eso no son los presupuestos serios señor damborenea son unos presupuestos de apaño de agonía del último momento que ojala sea verdad que sea el último momento que les queda a ustedes en el gobierno de españa nosotros queremos hacer una apuesta de verdad por el futuro de las pensiones

muchas más cosas que una consignación presupuestaria puntual para un año en los presupuestos del estado que es lo que ustedes han hecho nada más ustedes siguen sin garantizar la suficiencia financiera de los pensionistas a futuro no la hacen

para el año que viene eso sí siempre que ustedes me salven la cara políticamente y me aprueben los presupuestos no son los presupuestos los que ocasionan el problema de las pensiones en españa

que tenía problemas pero era solvente y que está empezando a dejar de serlo gracias a las actuaciones que ustedes están llevando a cabo eskerrik asko pastor jauna

cumplir el estatuto es incompatible con la constitución española aquel sí que fue sincero

gezurra bestela la cuenta de resultados niri beti gustatzen zait erabiltzea terminologia hori la cuenta de resultados zein da la cuenta de resultados del estatuto de gernika zein da la cuenta de resultados balantzea ona da

seis meses yo creo que es una fecha más que suficiente para que el gobierno español nos conteste y nos diga qué plan qué programa y qué calendario de traspaso de transferencias tiene

hau ezin da izan ere merchandising erako elementu bat me apruebas los presupuestos generales del estado

no comulga con el desarrollo estatutario y la manera de cumplir con las obligaciones de gestionar el autogobierno

es un mínimo de rigor en el tratamiento de los temas rigor que tiene que ser correspondido con idéntico rigor uste dut rigorea eta ardura dagokigula eta orain dela hori martxan jartzeko

egun on denoi hoy se propone a debate en esta cámara la cuestión del cumplimiento íntegro del estatuto de gernika será la sexta

acuerda exigir respecto al estatuto que fue aprobado en referéndum por la ciudadanía vasca

se remonta a julio de mil novecientos noventa y tres un acuerdo para fijar los criterios del parlamento sobre el alcance del pleno desarrollo del estatuto posteriormente en octubre del noventa y cinco con la aprobación sin votos en contra del informe sobre prioridades y negociación de las transferencia pendiente

se acordó reivindicar y exigir por respeto a la voluntad de la sociedad vasca

de conformidad con los principios que lo inspiraron una cuarta vez en julio de dos mil dos se hizo un dictamen elaborado por la comisión especial sobre autogobierno

y denunciaba la responsabilidad del gobierno central de este incumplimiento y una quinta vez

este parlamento se ratificó en las numerosas y reiteradas manifestaciones pasadas cinco veces y hoy vamos a comenzar

y bienvenida la exigencia del cumplimiento íntegro del estatuto pero seamos sinceras y sinceros de qué va a valer qué es lo que va a cambiar si hoy el estatuto de mil novecientos setenta y nueve treinta y ocho años después de su aprobación

no es por desconocimiento de quienes no tienen voluntad de que se cumpla es decir de los sucesivos gobiernos centrales no es porque no sepan qué es una ley orgánica no es porque no sepan que fue ratificado por la ciudadanía y no es tampoco porque no conozcan los cinco

que ratificó este parlamento al contrario saben todo esto pero tienen la voluntad de incumplirlo y esos gobiernos tienen un nombre y un apellido

y por el partido socialista son los que hicieron de este estatuto una bandera política durante años una bandera de las que llenan la boca pero no la voluntad

pero cabe preguntarse también si son los únicos responsables

que no son los únicos responsables de este incumplimiento hoy quienes van a votar a favor de este acuerdo el partido nacionalista vasco

y social del estatuto utilizándolo como moneda de cambio en sus cambalaches en madrid

cambalaches presupuestarios de investiduras de pactos de legislatura y un montón de ellos más hoy quien va a votar a favor de este acuerdo

lo reitera lleva meses hablando de aprobar los presupuestos a rajoy a cambio de la transferencia de nuevas competencias más aún en este en el que lleva décadas instalado el partido nacionalista vasco se puede pactar el traspaso de competencias con aquel a quien se acusa de ser el mayor peligro para nuestra autonomía curioso cuanto menos y de todos aquellos polvos estos lodos hoy treinta y ocho años después

no se explica por qué sigue incumpliéndose una ley que representa y cito literalmente resoluciones de este mismo parlamento la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del país vasco y constituye en consecuencia la norma institucional básica de que se ha dotado

como punto básico de encuentro de los diferentes proyectos políticos existentes en la sociedad vasca marco válido para la resolución progresiva de sus conflictos y contribución decisiva

y la convivencia pacífica o que también se añade representa el compromiso que nos debe unir a todas las que reivindicamos la legitimidad democrática de nuestras

de esta cámara pero lo hacemos nuestro sin problema alguno esto lo decían ustedes los partidos que se sientan en esta cámara explíquennos cómo a pesar de que se hayan alternado en el gobierno vasco de que haya habido mayorías diversas de que haya habido incluso el mismo partido gobernando en ajuria enea que en la moncloa

con nuestra norma fundamental incumplida mejor aún explíquenselo a la ciudadanía vasca

este debate va a ser un cruce de reproches va a ser un ajuste de cuentas entre unas y otras de acusaciones cruzadas de quién es el principal responsable de este incumplimiento

hoy vamos a escuchar aquí una solución real y eficaz para acabar con esta situación hoy alcanzaremos el sexto acuerdo parlamentario pidiendo el cumplimiento íntegro de nuestro estatuto pero por desgracia todo hace pensar que no valdrá más

veces anteriores y espero equivocarme porque me pregunto qué hacer ante esta situación qué decir siendo una coalición que acabamos de llegar a esta cámara

ofrecer la posibilidad de conformar una mayoría lo más amplia posible con un planteamiento lo más sensato posible esa es nuestra humilde aportación hoy haber sabido

y de ahí que hayamos transaccionado con eh bildu una enmienda y agradezcamos la receptividad queremos poner en valor esto mismo la posibilidad de llegar a acuerdos saben cuál es la mayor diferencia que se ve entre los primeros acuerdos que he citado y los últimos el grado de consenso que concitaban

los primeros se inspiraban en el pacto de ajuria enea los siguientes nacieron más condicionados

y líderes políticos del partido nacionalista vasco que lo daban reiteradamente por inservible o muerto

este pacto decía literalmente no podemos dejar de constatar la preocupación que se ha ido produciendo en sectores de la sociedad vasca

han correspondido a lo que pudieron esperar cuando se aprobó el estatuto esta preocupación que no invalida los logros conseguidos en estos ocho años de desarrollo estatutario debe servirnos de estímulo para intensificar la disposición al diálogo y al acuerdo

para la resolución de los conflictos políticos y para el mantenimiento de la confianza depositada en el estatuto sinceramente vuelvo a reiterar hoy nosotras firmaríamos

creemos que hay que volver a una disposición sincera de diálogo no solo para asegurar el desarrollo íntegro del estatuto la misma disposición de diálogo y acuerdo debe ser la guía que nos valga para alcanzar un acuerdo plural amplio

para actualizar nuestro autogobierno un acuerdo que es incompatible con los llamamientos a conformar bloques que se han oído en los últimos meses por algún portavoz

un acuerdo que es incompatible con el establecimiento de líneas rojas que la sociedad vasca no comparte como hacen otros partidos como el partido socialista o el partido popular

ni otras cuenten con elkarrekin podemos en estas estrategias que no aportan nada positivo a la ciudadanía vasca no es una cuestión de ser ingenuas llamar al diálogo y al acuerdo treinta y ocho años después del incumplimiento no es un brindis al sol es constatar la única vía posible de avance

un canto al buenismo y que debe tener una base de exigencia real de exigencia a quien ahora mismo está encasillado en el no de exigencia al gobierno del partido popular

que los votantes y apelaba a que nos han elegido a los diferentes partidos

en esa misma línea nos encontramos nosotras pero también tenemos que entender que la negociación de esas transferencias pendientes no puede ser un cambalache político como el que enarbola aún hoy el partido nacionalista no puede ser una petición de más competencias por tener más competencias como hace el pnv hoy es imperativo recuperar el valor social y político del estatuto de gernika

su valor entre la ciudadanía vasca y para ello mejor diría que casi el único camino sería explicar que ese autogobierno debe necesariamente ser la base

de la ciudadanía para blindar sus derechos no el intento de acaparar poder de algunos eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea

buenos días pues bien como decía la representante de podemos es cierto la sexta vez

en esta ocasión la propuesta la trae euskal herria bildu

de defender el cumplimiento de la ley otra cosa son sus intenciones

las especificadas en la parte dispositiva que eleva debate son literalmente denunciar el incumplimiento del estatuto

y que ese cumplimiento no sea un condicionante para el debate abierto en la ponencia de autogobierno perfecto

a eso añadimos nosotros por pura lógica que de acuerdo con los procedimientos legales vigentes algo que por cierto está recogido en el acuerdo parlamentario que dio lugar al nacimiento de la ponencia de autogobierno respecto al ordenamiento jurídico vigente

a nosotros nos parece que las leyes no son inmutables es verdad se pueden cambiar

salvo que se quiera jugar al conflicto y a la frustración y no es nuestro caso lo primero que hay que decir es que el grupo socialista no va a poner peros a quienes pidan cumplir la ley venga de donde venga incluso de ustedes incluso cuando viene de la corriente política que durante decenios se negó a aceptar esa ley de quien apela en este debate a la constatación de que

de pacto político para construir un país entre todos a la ley que ha hecho posible que contemos con el concierto con osakidetza con lanbide con la rgi con la escuela pública y con el derecho a la vivienda

cuando ustedes no querían aceptar el estatuto como un instrumento válido

un grave déficit que venimos arrastrando y en el que todos tendremos algo que denunciar y todos tenemos responsabilidad y digo todos sin excepción los de allá y los de acá los socialistas no vamos a escatimar reproches del actual gobierno de españa a su falta de visión política

a su recurso a la judicialización de aquello que debe resolverse en una mesa de negociación

le vayan a faltar tampoco reproches a los gobiernos socialistas que hubo en españa que también tenemos nuestra parte de responsabilidad pero también aquí

los nacionalistas declarados dirigirán sus dardos a cualquier gobierno de españa en general intentando obviar su cuota de responsabilidad por determinadas actitudes pasadas

por el intento de acoso y derribo a este marco de convivencia durante decenios en este país

pero integra fuerzas que han tenido responsabilidad también en este asunto porque también su coalición incluye alguna fuerza que ha participado en el gobierno vasco pero vamos a ir analizando lo que queda y lo que no queda para saber de lo que estamos hablando

el informe elaborado por el actual gobierno porque así lo acordamos los socialistas con el pnv

también por gobiernos en los que no es casualidad estábamos los mismos partidos que estamos ahora el informe comienza haciendo un repaso de lo que ha ocurrido desde el informe

y constata más de una veintena de traspasos de aquel hasta hoy de competencias plenas y de determinados servicios

o que era una carta otorgada a pesar de aquellas declaraciones y a pesar de que durante la primera década

específicamente se planteara una ruptura absoluta desde el gobierno de ibarretxe el estatuto seguía y sigue muy vivo tanto que permitió a pesar de todo que sin necesitar ni una sola transferencia más en dos mil ocho consiguiéramos que la renta de garantía de ingresos

subjetivo o que en el dos mil quince sin necesidad de ninguna transferencia acordáramos que la vivienda estuviese garantizada a quienes no tenían suficientes recursos es decir que a pesar de los torpedeos desde fuera o desde dentro instauramos esos derechos nos hicimos cargo de las políticas de investigación

y a partir de ahí en el informe último se aportan treinta y siete fichas que no treinta y siete transferencias pendientes hay algunas que se refieren a competencias reales

como las referidas a prisiones no a la política penitenciaria a prisiones y a la gestión económica de la seguridad social y sus derivadas y el grueso del trabajo son materias y servicios que pueden ser transferidos como ferrocarriles o aeropuertos

títulos competenciales establecidos como tal en el estatuto sino que se pueden conseguir a través de convenios y de acuerdos y pueden hacerse si así se acuerda porque así lo permite el estatuto la constitución y la propia interpretación que hace el tribunal constitucional en diversas sentencias y directivas europeas que corrigen competencias nosotros defendemos

de manera más eficaz desde aquí desde euskadi porque cuando hablamos de autogobierno además del respeto al estatuto los socialistas preferimos el discurso de eficacia al del agravio hablar de utilidad para mejorar los servicios de la gente

adecuación a la realidad y sentencias del constitucional adecuación a la normativa europea concreción sobre competencias definidas en el estatuto y diálogo con el gobierno de españa

en la placidez de la mayoría absoluta durante cuatro años ha ignorado en euskadi y en otros territorios y que ha servido como mejor alimento del independentismo para situarse en una

lo hemos dicho en alguna ocasión y lo repetimos el pp no debe ponerse el estatuto en un pin que está muy bien se lo tiene que creer de verdad no vale pedir que se cumpla la ley en cataluña y no cumplirla en euskadi no vale torpedear el autogobierno ni parapetarse permanentemente

tampoco le vale eludir su responsabilidad la mínima que es la ausencia voluntaria de sus escaños durante muchísimo tiempo en este país y la máxima

estaba en la aniquilación de quienes estaban construyendo país con las competencias en su mano yo me alegro sobremanera de su rectificación y se lo reconozco

en este camino nuevo el proyecto de convivencia que supuso el estatuto ha sido hasta ahora el mejor que hemos sabido hacer una ley marco que defendimos en su origen tres de las corrientes políticas que hoy están representadas en esta cámara

el partido nacionalista vasco y el partido comunista otros no estuvieron no quisieron estar o incluso se opusieron ferozmente y aquel espíritu y aquel pacto de convivencia es el que apelamos hoy

no nos duelen prendas no podemos aceptar que eso haya sido de forma unilateral como dicen ustedes en su primer punto que ha sido el bloqueo ha sido de forma unilateral por los gobiernos de españa no no

por parte de los responsables nacionalistas ni podemos aceptar tampoco su cuarto punto donde se hace referencia a un respeto

a lo que dice la constitución de la propia ponencia de autogobierno con respeto al marco jurídico vigente

en la transacción en cualquier caso nosotros seguimos apelando al diálogo entre las dos administraciones para completar

e invitamos también a todas las fuerzas a poner al día nuestras herramientas para avanzar en la euskadi social y con el aserto final de cumplir la ley incluso para cambiar la ley

señor lehendakari señor consejero voy a intentar ser muy breve por dos motivos fundamentales primero porque es verdad que esto se ha debatido hasta la saciedad y no parece que haya grandes novedades que podamos aportar unos y otros segundo porque alargando el debate probablemente enteremos en ese especie de reproches de las que auguraba el señor pastor y le puedo asegurar que no va a ser

y tercero porque lo que tengo que decirle es probablemente lo pueda decir en muy poco tiempo

porqué no vamos a respaldar esta proposición no de ley ni la de origen ni la que han llegado ustedes

elkarrekin podemos permítame que comparta con usted aunque le importe poco una sorpresa particular y es que es notable sobre todo viéndole

que esta defensa encendida que hace bildu en estos momentos del cumplimiento del estatuto de autonomía máxime cuando la campaña de expresiones que me parecen insisto

especialmente relevantes cuando usted dice fueron escépticos literalmente ha dicho usted

hombre llamar escepticismo a la posición política mantenida durante décadas por la

al estatuto de autonomía suena cuanto menos curioso

me parece razonable el que pasa toda su vida pensando de la misma manera pues probablemente pueda

de esa actitud pero tampoco vamos los demás a aplaudir con las orejas cuando dice usted que fueron escépticos algo más que escepticismo

en torno al estatuto de autonomía y dice que esto es mejor también que no tener nada

décadas después mucho daño causado también

euskal herria bildu se sume a la mayoría de esta cámara y a la mayoría social como usted ha reconocido también

euskal herria bildu dice literalmente reconoce literalmente algo que es obvio verdad pero que les ha costado reconocerlo décadas hombre el estatuto de autonomía fue ratificado por los ciudadanos y ciudadanas vascos en su día dice

ciudadano al que ustedes han dado la espalda

que pretendía no solo a través de la violencia derrocar

me parece muy relevante sus manifestaciones hoy aquí y el cambio radical de ciento ochenta grados de la izquierda abertzale que usted representa en esta materia es algo que insisto seguro que a todos en buena mayor o menor medida pues nos alegra

su discurso por los cuales no vamos a defender no vamos a apoyar esta iniciativa en segundo lugar es porque

en el cuerpo también de la misma no son ciertos cuando se dice literalmente

que diferentes gobiernos de españa han bloqueado sistemáticamente la ejecución o la concreción de determinadas transferencias pues eso tampoco es cierto y me sumo a lo que ha dicho el señor pastor aquí probablemente haya responsabilidades compartidas y es verdad que cada uno va a arrimar en este debate el ascua a su sardina pero no es menos cierto que hay determinadas

nunca ha interesada a los sucesivos gobiernos de euskadi mientras eta estaba asesinando no interesaba convertirse en los carceleros

por tanto el partido nacionalista vasco cuando ha ocupado las responsabilidades de gobierno en euskadi nunca ha reclamado la transferencia de prisiones como uno de los ejes del autogobierno vasco al menos yo que algún año llevo en política nunca le he oído al partido nacionalista vasco decir que el autogobierno de euskadi y el futuro de que nuestra entidad dependía en buena medida de tener la transferencia de prisiones o no es algo que políticamente era más o menos una patata caliente y nunca ha interesado

nunca ha interesado tampoco en los términos acotados por el tribunal constitucional de hecho hace pocos meses también en esta cámara una enmienda presentada por el partido popular en la que se reclamaba que se negociara esta transferencia insisto la de seguridad social en los términos acotados por las leyes y también por las sentencias del tribunal constitucional

creíble la voluntad yo no me la creo por mucho que usted la expresa aquí y tampoco por no ser cierto lo que afirman

esta iniciativa lo que sí es cierto es que aquí hay una voluntad política legítima creo que es una voluntad política y además mayoritaria en esta cámara que lo que pretende es cargarse el estatuto de autonomía de gernika

constituida en esta cámara que lo que pretende es alumbrar un nuevo estatus jurídico político y para defender esa posición para defender esa posición que se concreta en cargarse el estatuto de autonomía y alumbrar una cosa nueva interesa expandir la idea interesa en seguir insistiendo

yo quiero aprovechar también esta intervención ya estoy incumpliendo mi primer compromiso que era el de ser breve es que me vengo arriba cuando vengo a la tribuna quiero aprovechar esta intervención para pedirles de verdad tranquilidad

nosotros estamos convencidos me consta que algún miembro del gobierno probablemente también de que hay margen para el acuerdo para seguir avanzando en el desarrollo del estatuto de autonomía que hay margen y que de hecho eso está en la agenda para que la comisión mixta de transferencias en el seno de la comisión mixta de transferencias que es donde se hablan de estas cosas porque no solo se hablan de eslóganes el señor erkoreka lo sabe bien

y de análisis técnico en buena medida también sobre lo qué significa la transferencia de una competencia o no en términos fundamentalmente de orden económico

alumbrar acuerdos en los próximos meses y

que el diálogo y el acuerdo es lo que no va a faltar en los próximos tiempos diálogo y acuerdo enmarcado como no puede ser de otra manera en la propia constitución y en el propio estatuto de autonomía y también

sentencias del tribunal constitucional por eso yo les animo también encarecidamente a rebajar el dramatismo dramatismo que en algunas intervenciones he tenido oportunidad

el ochenta por ciento siendo generosos no afecta ni en nuestra identidad ni al autogobierno y lo que es más importante no afecta al servicio que se presta al ciudadano no afecta

además llevamos meses llevamos una trayectoria de éxitos en acuerdos

llevamos un tiempo largo de acuerdo en diversas materias entre los dos gobiernos entre el gobierno vasco y el gobierno

acuerdos y entendimiento que insisto también van a seguir produciéndose en los próximos meses y además no quedan treinta y siete transferencias pendientes

pero el propio informe reconoce que no quedan treinta y siete transferencias pendientes porque es el propio informe el que se enmienda

no son transferibles lo reconoce el propio informe del gobierno vasco pero es que entre esas treinta y siete transferencias está pues el parador nacional de hondarribia hombre está bien es un edificio maravilloso y magnífico en una ubicación excelente y además un destino turístico

de la titularidad del parador de hondarribia y así podríamos seguir degradando

numerosas competencias supuestamente pendientes que aparecen en ese informe y además si hay diferencias se resuelven mire recientemente el tribunal constitucional

ha fallado a favor del gobierno vasco a la hora de ejecutar la transferencia de dos líneas de ferrocarril que estaban contempladas como interés general

a la comunidad autónoma del país vasco como así va a suceder ese tribunal constitucional que está comprado señora ugarte y a veces está menos comprado o a veces no está comprado a veces está comprado por otro gobierno entiendo

de un delito en este caso de prevaricación de que están comprados esto es lo que le permite a usted nuestro estado de derecho lo que no quiere decir que todo lo que se diga en esta tribuna ni tan siquiera lo que diga yo sea verdad

por eso las diferencias en un estado de derecho como el nuestro cuando existen discrepancias a la hora de hacer una valoración

y no cuando me da la razón acierta y cuando me la quita

al gobierno vasco albricias albricias termino el estatuto de autonomía

magnífica el estatuto de autonomía no solo es una historia de éxito para los vascos

en términos políticos que también estamos aquí sentados y tenemos la responsabilidad de legislar sobre aspectos que afectan directamente

de aspectos de lo que importa a los vascos lo decidimos aquí en su inmensa mayoría

que de éxito futuro lo que tenemos que hacer entre todos

para lo que el partido popular ofrece ha ofrecido y ofrecerá su colaboración es que se siga cumpliendo el estatuto se siga desarrollando en los términos establecidos por la ley y por las sentencias del tribunal constitucional muchas gracias y perdón por haber faltado

debe constituir la primera condición y base para poder construir

que es mucho solo el régimen económico de la seguridad social solo la gestión del régimen económico de la seguridad social

el presupuesto del gobierno vasco el actual luego estamos hablando de cifras mayúsculas aparte de otras competencias sin trasferir que todavía restan en segundo lugar

recuperar el poder público reconocido y transferido pero que ha sido

y condicionado y el tercer punto sería ampliar el quantum competencial me he referido a las políticas públicas con competencia legislativa plena en esta cámara evidentemente para articular

y también del principio democrático la adicional de la constitución y el principio democrático una nueva relación política el reconocimiento de un amplio elenco de competencias a parte de rescatar

y evidentemente fuera de lo que puede ser el ámbito de afección del título octavo de la constitución ese es el planteamiento

ha hecho y ha puesto encima de la mesa de la ponencia de autogobierno hay una cuestión que ha sido común en la referencia que han hecho

en la enmienda la enmienda transaccionada que por cierto vamos a votar ya pueden decir lo que quieran pero evidentemente

alguien se podrá poner a la par pero por delante del partido nacionalista vasco difícil es muy difícil demostrar en los últimos treinta y ocho años que alguien haya estado

del estatuto pero como dicen por ahí que no debe tener o el cumplimiento del estatuto no debe estar sujeto a otros acuerdos y variables

porque a lo largo de los treinta y nueve años ha habido variables

por referéndum el veinticinco de octubre del setenta y nueve bien

las primeras elecciones se celebran en abril sale un gobierno vasco

constituye el gobierno y a los diez meses hay un golpe de estado que tuvo que ver con la configuración del estado de las autonomías como se ha podido comprobar con posterioridad con los relatos auténticos de las intenciones de ese golpe de estado tanto referido a euskadi como a cataluña a otras nacionalidades es una variable

que se han sucedido en la responsabilidad de la gobernación del estado y que aquí han tenido una capacidad parlamentaria

la configuración de mayorías y de programas de gobierno como se ha encargado de reflejarlo el señor pastor porque el partido nacionalista vasco

que configurábamos y teníamos a una izquierda abertzale entonces en otras estrategias

entre esas estrategias políticamente estaba la de combatir el estatuto y hoy tenemos una metamorfosis habrá que ver la autenticidad de las decisiones porque hoy estamos hablando de eh bildu no estamos hablando

pudiendo votar unas serie de opciones no lo hicieron en su momento o cuando entendían que el gobierno vasco se queda en minoría y ellos tenían que atender a otra estrategia

directamente nunca ha negociado el estatuto el año pasado todos esos acuerdos a los que se refieren han sido las instituciones

el partido nacionalista vasco es verdad porque el estado tenía definido y decidido no cumplir el estatuto

el discurso hasta el discurso del cumplimiento del estatuto ojalá pudiéramos tener posibilidad no solamente de llenar el estatuto es lo que contemplaba inicialmente como de sentar las bases para un próximo estatus ojalá pudiéramos tener la oportunidad pero el partido nacionalista vasco

el partido nacionalista vasco es llamado cuando el que

en españa necesita votos sino no te llaman esa es la realidad porque no hemos tenido aquí tampoco nosotros una mayoría

de los autonomistas o federalistas o de los soberanistas o independentistas no hemos tenido ese apoyo no lo hemos sentido no hemos tenido ese apoyo entonces tú cuando vas a madrid y aprovechas la oportunidad evidentemente no está pelechando para el pnv estás poniendo encima de la mesa

o lo haces o no hay votos y lo hacen

pero negocia el gobierno vasco las instituciones vascas no el pnv el pnv aprovecha la oportunidad para que en un estado de necesidad que tenga el gobierno español de turno podamos seguir completando el estatuto porque las consecuencias del incumplimiento son graves

la estrategia de no cumplir el estatuto no solamente hay una merma material hay una desconfianza

hacia el instrumento del estatuto ni te cuento si se combate pero es que afecta de forma directa y negativa

gracioso o sea decir que el estatuto goza de buena salud

no acaba de parirse o bien porque no se cumple

me remito a la cuenta de resultados la cuenta de resultados es esaten duzue egin duzuela

menudos goles por la escuadra por arriba por abajo por la esquina izquierda por el lateral derecho o sea

estoy convencida y me reafirmo que hoy algunos partidos de esta cámara serían incapaces de firmar el pacto de ajuria enea y eso que han pasado exactamente treinta años desde que se firmara en enero de mil novecientos ochenta y ocho

se dice todos los firmantes del presente acuerdo nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad a tal efecto a través de una comisión institucional el parlamento vasco se procederá

a fijar con el mayor consenso posible los criterios del parlamento sobre el alcance del pleno desarrollo del estatuto

dice es la voluntad mayoritaria del pueblo a través de sus representantes legítimos

como instrumento de autogobierno y decidir en su caso su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio estatuto y en la constitución

el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que de acuerdo con las disposiciones adicional primera de la constitución y única del estatuto

corresponder señor pastor usted ha hablado aquí

tenemos la mayor autonomía de nuestra historia la mayor descentralización

que se gestiona desde euskadi que hay un tanto por ciento que se está cumpliendo y sí y es cierto que la mayoría de esas cuestiones

desde elkarrekin podemos las ponemos en valor si bien hay que recordar varias cosas primero que felipe gonzález

de terrible recuerdo en euskadi se comprometió a que el estatuto estuviera desarrollado completamente en mil novecientos noventa y siete curioso

para asegurar el bienestar de la ciudadanía vasca sin lugar a dudas son también otras cuestiones que ahora vamos a firmar la primera que una ley no permite cumplimientos a medidas ni permite cumplimientos en tantos por ciento que el desarrollo del estatuto la negociación que se precisa

ni a otras nos pertenecen a todos y a cada una de las ciudadanas y ciudadanos vascos sin excepción y la clave para el futuro es que así sea que este estatuto u otro futuro no sea sentido como algo de parte algo que pertenece más a unas que a otras que este estatuto u otro futuro como al que aspiramos en elkarrekin podemos el de todas las vascas sin excepción la segunda que la voluntad de la ciudadanía vasca es la única que quita y da razones

que ellas es el comienzo y el final de los acuerdos que tomemos los partidos políticos

este parlamento está trabajando en un nuevo acuerdo con este fin y tenemos que esforzarnos por recuperar el sentido amplio plural y transversal que lo haga posible

seguro que usted conoce esa frase de maldita hemeroteca le voy a citar literalmente las palabras del lehendakari ibarretxe en esta cámara estoy segura

máter del soberanismo de su partido le resultarán una referencia válida sabe qué dijo el diecisiete de octubre del dos mil en una comparecencia a petición propia en este mismo parlamento

el proceso de transferencias aún sin culminar ha estado condicionado permanentemente a la obtención de contrapartidas políticas que nada tienen que ver con el cumplimiento de una ley orgánica simplemente ni más ni menos ha sido un voto en unos presupuestos un voto en una ley no presentación de una enmienda de totalidad lo que ha constituido el eje vertebral

que ha permitido desarrollos puntuales del estatuto en determinados momentos esto es lo que ustedes no solo han aceptado me gustaría terminar mi intervención gracias esto es lo que ustedes no solo han aceptado sino que han legitimado como forma habitual de tratar nuestro estatuto

siguen haciendo hoy eso es lo que ustedes han defendido y siguen defendiendo para la aprobación de los presupuestos generales del estado

y nuestro autogobierno hayan perdido legitimidad social y política es lo que no debe seguir ocurriendo y es lo que debe quedar erradicado de la política vasca

ha sido un escándalo que para conseguir algunas transferencias hemos tenido que andar

en madrid y si no le es suficiente usted mismo

que el estatuto fue una carta otorgada me gustaría que se aclarase es fruto de la voluntad libre y democrática de la ciudadanía vasco o es una porque usted mismo hablaba antes de que van por delante del estatuto no sé si van por delante por detrás a la izquierda arriba abajo o a la derecha

compiten ustedes contra sí mismos y que nosotras siempre vamos a estar al lado de la ciudadanía y señor

usted anunciaba noticias positivas sobre transferencias lo hace además coincidiendo con la negociación de los presupuestos generales del estado qué casualidad

el partido nacionalista vasco y el partido popular ya tienen hecho un acuerdo por mucho que el partido nacionalista lo niegue una y otra vez

tendrán ustedes el camino abierto para hacer público lo que ya han acordado a escondidas hoy necesitamos otra forma de hacer radicalmente diferente necesitamos que autogobierno sea sinónimo de bienestar social de derechos sociales

en nuestra tierra necesitamos que sea el acuerdo de todas que deje de ser un lugar que no se celebra

que se cita con la boca pequeña un texto incumplido o que genere broncas necesitamos que el autogobierno sea un nuevo estatuto nos una a todas las vascas

necesitamos un acuerdo inclusivo y tiene que ser en un nuevo estatuto

del marcador que no me parece razonable yo creo que este es el día del ongi etorri a bildu y al mundo de batasuna por venir al estatuto sinceramente yo me alegro me sorprendo

comparto con ustedes parte de la crítica de la falta de desarrollo pero me gustaría que harían también la parte autocritica que les toca ustedes combatieron

sino violentamente incluso el estatuto porque les parecía que era un agravio a la soberanía del pueblo vasco palabras concretas que dijeron ustedes ahora rectifican y a mí me parece

creo que el problema de traer las réplicas escritas de casa tiene estos problemas usted ha venido aquí no a contestar sino a repartir para todo el mundo pero en fin cuando el criterio consiste en poner un poquito de culpa a cada cual eso distrae mucho pero no ayuda nada

de las gestiones del gobierno socialista también cuando los ha habido en la gestión del estatuto pero en fin yo comprendo que cuando se llega por primera vez a un sitio pues se está un poquito descolocado que haya cosas que uno no conoce pero ya aprenderán

y en cualquier caso yo les quiero anunciar que nosotros vamos a apoyar la propuesta pero no en su totalidad como la han planteado

nosotros no podemos aceptar cuando se dice que el bloqueo se debe de forma exclusiva a la actuación unilateral del gobierno no es verdad ha habido también obstáculos en la parte vasca muchas veces a la gestión de determinadas transferencias

daba una idea de cuál era lo que se había que transferir de la seguridad social que no tiene nada que ver con lo que ahora se recoge

claramente que se hiciera aquella transferencia por lo tanto no podemos aceptar ese tema y pediremos la votación por puntos como no podemos aceptar

ningún derecho deja de tener límites y este tampoco y además basándonos en que la ponencia de autogobierno

y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente pues nosotros

ni el punto cuatro y pediremos la abstención y

en su anterior intervención creo que incluso literales palabra por palabra no pero en fin solamente una salvedad desde el cariño señor egibar

de este gobierno y había un gobierno socialista en españa el pnv negoció

al margen del gobierno vasco las políticas activas de empleo por cierto en una negociación de la que ahora nos arrepentimos todos también ustedes ahora que les toca negociar digo por poner las cosas en su sitio

no no seré breve no solo eso señor pastor haciendo

antes ha dicho que nadie les había adelantado nosotros lo acordamos con ustedes para hacer lehendakari a patxi lópez reclamar la transferencia de las políticas activas de empleo

que hizo lehendakari a patxi lópez y que obtuvo el acuerdo del partido popular porque creíamos que las políticas activas de empleo en el marco establecido también

podía ser ejecutada sin ningún problema por cierto diez años después de lo que fue transferida a otras comunidades autónomas aquí llegamos tarde también por una falta de voluntad política a lo largo de diez años

en la manera de ejecutar la transferencia pero no por una cuestión dramática de acoso y derribo

pasaron cosas entre feas y poco edificantes también

una buena gestión de hecho lanbide lleva siendo noticia desde hace años desgraciadamente por noticias de mala gestión la ejecución de la transferencia no garantiza que se ejecute bien probablemente se pueda perjudicar incluso

las transferencias la ejecución de una determinada materia no se realiza para satisfacer el ansia política de ninguna formación ni tan siquiera la voluntad política de un gobierno

que esa competencia residida en una comunidad autónoma es decir fruto de una descentralización

la que existe en nuestro estado iba a provocar y a ofrecer un mejor servicio al ciudadano

entre todos pero con singular interés el gobierno capaces de corregirlo señora

de buena salud y usted se lamenta diciendo que no goza de buena salud abundando en su defensa sobre el estatuto de autonomía insisto nos parece razonable y hacía mención al señor urruzuno y al señor arzuaga con todo el afecto y respeto como aguerridos independentistas que sentados a su lado tienen que ver cómo

ultranza del estatuto de autonomía por lo tanto de nuestro ordenamiento constitucional insisto me parece nos parece una buena noticia

más allá de dos o tres competencias que sí son singulares en cuanto a su dimensión política y económica

de prisiones aunque es verdad que quede poco porque la seguridad tanto externa del traslado de presos la educación la sanidad ya está transferida y de hecho la ejerce el gobierno vasco lo que queda por trasferir perdónenme la expresión que es poco técnica pero creo que es muy gráfica queda por transferir

y los muros pero bueno tiene una dimensión política innegable sobre todo

la de la seguridad social que hay que acotar también las condiciones y las características técnicas y acordar en la comisión mixta de transferencias en su caso las condiciones en los que se transferiría en su caso el resto de competencias son competencias

lo que le decía es que no afectan a nuestra singularidad no afecta a nuestro autogobierno y por tanto no afecta al servicio que se presta al ciudadano salvo que se quiera decir

nuestro autogobierno o que no tener los seguros agrarios o la inspección pesquera en aguas territoriales

y luego podríamos entrar a valorar también si transferir el patrimonio del estado en este caso

lo que queda no sustenta ese agravio al que ustedes se apoyan

para avalar y para defender la tesis independentista para

de un nuevo estatus jurídico político a imagen y semejanza de lo que se intentó en la época del ex lehendakari ibarretxe no vale no vale alegar

por lo que le acabo de decir y segundo porque se va a seguir avanzando confíe señor egibar

de verdad mire el horizonte con un poco de optimismo pero no como un acto de fe

de su corazón también le alegra este acuerdo y ese entendimiento que existe

que siga produciéndose por el bien de todos y singularmente de los ciudadanos entre el gobierno vasco y el gobierno de españa

porque a la portavoz de podemos le diré de elkarrekin podemos le diré que como futuróloga poco éxito espero que como parlamentaria tenga mucho más pero esto que usted dice que está sobre la mesa de negociación entre el partido nacionalista vasco y el partido popular entre los dos gobiernos no es tal esto de que mañana o pasado

en cualquier caso de lo que se trata es de aquí entre todos consigamos

hablar de las cosas como son y cuando hablamos de transferencias pendientes y de la salud del estatuto seamos por lo menos sinceros y esto ni les va impedir a ustedes ser independentistas ni al señor egibar querer cargarse el estatuto de autonomía y

por supuesto estoy de acuerdo con lo que dijo ibarretxe con lo que dijo arzalluz y por el momento con lo que dije yo también

nosotros estamos hablando de promover un nuevo estatus por supuesto que valoramos el autogobierno conseguido

y las interpretaciones restrictivas que se han practicado

reiteradas del constitucional y el movimiento involucionista que empieza a alumbrar también en ciertos foros políticos en el estado español eso es así pero estamos decidimos a ir hacia delante he dicho antes muchas veces hemos

pero no en soledad y cuando digo solos hemos tenido acompañamiento también de ezker batua que después no sé qué pasa cuando llegan a madrid que todo muta esperemos que no pase eso con podemos y que podamos alumbrar también un acuerdo entre todos

no hemos tenido ni una limitación hemos tenido suficiente tiempo para poder escribir poner negro sobre blanco de qué es lo que piensa cada formación política de cara al futuro de este país

que desde la perspectiva de no solamente sostener sino aumentar consolidar el autogobierno tenemos que gozar como pueblo de instrumentos que ayuden para que esa personalidad política como pueblo se pueda asegurar también en tiempos futuros desde ese reconocimiento y por supuesto teniendo en cuenta la sociedad a la que servimos

jóvenes y mayores que tienen derechos civiles económicos y sociales y tenemos que asegurar desde el conjunto de esta cámara con las posiciones de cada cual intentando hacer la síntesis mayor que seamos capaces de obtener con el mayor consenso posible

sin vetos y ver hasta dónde alcanza ese consenso y de eso vamos a tener prueba

si trabajamos como es debido o el trimestre que sea del año que viene

eskerrik asko presidente andrea muy buenas otra vez a todos

de abordar este debate intentando aportar datos y por lo tanto también desde la serenidad compartir reflexiones e intentar que la discrepancia pues

edificante posible dentro de las discrepancias que como es notable y conocido por todos existen pero es una materia sobre la que se puede discutir sobre la que se puede debatir con serenidad y explicar las posiciones de unos y de otros sin que insisto

poco edificante comenzaré diciéndoles que nos hubiera gustado

pero la realidad es que estamos hoy aquí insisto más tarde de lo que nos hubiera gustado

en las que a pesar del tiempo transcurrido nos sigue pareciendo relevante y necesario y oportuno su debate por qué

se introdujo la figura de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico fundamentalmente fueron por cuatro razones la primera de ellas porque se identificó que existió una continúa exposición de la sociedad a los crímenes

desde terrorismo hasta los asesinatos más abominables de menores de discapacitados de mujeres violadas

respuesta punitiva a estos crímenes concretos en tercer lugar porque se identificó

contaban con esta respuesta penal ante estos crímenes de especial gravedad y que en españa no se contaba con esta respuesta para castigar

estos crímenes que seguro que todos coincidimos que son de extremada gravedad en cuarto lugar porque desde el año dos mil once el partido popular venía defendiendo

en el código penal por lo tanto fue el año dos mil quince después de estos argumentos genéricos y después de esta voluntad expresada y esta posición política fijada por el partido popular ya en el año año dos mil once cuando tuvimos oportunidad cuando el gobierno del partido popular

en nuestro ordenamiento jurídico quiero decirles

su contenido tasada y definida en cuanto a qué y en cuanto a cómo aplicarse se aplica potencialmente se aplica en su caso a una lista de ocho a una lista cerrada de ocho delitos concretos cuya gravedad justifican por sí solos su inclusión por ejemplo

especialmente vulnerables por razón de su edad enfermedad o discapacidad física o mental

supuestos en los que un tribunal impondría esta pena privativa de libertad por lo tanto es una pena nosotros creemos estamos absolutamente convencidos

para los que se contempla y además es una pena revisable

así lo demuestran tras el cumplimiento de una parte mínima de la condena

puede ser se puede revisar habiendo la posibilidad de que el penado obtenga siempre y cuando y esto es lo más relevante siempre y cuando

garantías de su reinserción efectiva por lo tanto es una pena que dando cumplimiento al mandato constitucional posibilita la reinserción

el estado tampoco se desentiende del preso si el penado consigue salir de la cárcel será porque ha logrado las capacitaciones adecuadas para reinsertarse

si no ha obtenido esas capacitaciones para reinsertarse se evita que salga a la calle quien no está en condiciones de obtener esa reinserción en la sociedad impidiendo por ello y esto es muy relevante que vuelva a reincidir en sus crímenes

tristemente en numerosos casos en nuestro país como el violador del ascensor el violador del estilete el violador del portal y el caso

por ejemplo entre otros además también como decía antes es una figura avalada por el derecho comparado

no nos vamos a ir a otros ámbitos geográficos italia reino unido grecia

suiza dinamarca finlandia suecia noruega ya la tienen implantadas

desde hace décadas y además ha sido impulsada

fue impulsada por formaciones políticas de diferentes sensibilidades en francia

por ejemplo en otros países nórdicos también gobernaban partidos socialdemócratas y oiga pues parece que no supuso

en la que hay diversas personas de diversas ideologías y partidos políticos de diversa condición y gobiernos también

en sus ordenamientos jurídicos además y esto también es relevante

y donde fija el mismo periodo de revisión inicial que en españa en torno a los veinticinco años la corte penal internacional

por el consejo general del poder judicial por el consejo de estado y por el tribunal europeo de derechos humanos que en reiterada doctrina que en reiterada doctrina afirma literalmente que la prisión permanente revisable es legítima y compatible con la convención europea de derechos humanos siempre que sea revisable

de liberación no podemos tampoco obviar como otros argumentos a favor

que cuenta esta medida con un importante aval y respaldo social esta figura

o adscripción política es decir de una manera transversal avala a través de sucesivas encuestas y sondeos de opinión esta figura permítame que le recuerde la encuesta del observatorio de la actividad de la justicia

cifra en ochenta y dos por ciento de respaldo social la prisión permanente revisable

lo deja en setenta y cuatro por ciento de respaldo social una encuesta de metroscopia del año dos mil quince para el país lo cifra en sesenta y siete por ciento y la última encuesta de gad tres de dos mil ocho para abc

no es un apoyo que se produce en un momento puntual fruto de

sino que es un apoyo mayoritario y constante y continuado a lo largo del tiempo llevamos más de una década esta país lleva más de una década debatiendo sobre esto y por lo tanto parece que el debate se ha podido producir

y se ha valorado con reposo por parte de los ciudadanos a parte de por los políticos como ustedes

en el marco de una reforma más amplia y en todos estos años desde el año dos mil quince que tampoco han pasado veinte años pero han pasado unos cuantos solo ha habido una

procesado por el asesinato de sus dos hijas de cuatro y de nueve años fue el asesino de la radial utilizando una sierra radial eléctrica y un cuchillo de cocina y tras haberlas drogado para evitar que pudieran defenderse

el único ciudadano la única persona que ha sido condenada con este figura penal

aunque es difícil a veces discernir las entrañas o el corazón de la cabeza a la hora de referirse

si hay una pena proporcional a crímenes semejantes

la pena más grave que nuestro ordenamiento jurídico permita debe ser implementada a estos asesinos

penal más dura posible y las mayores garantías de no reincidencia es lo que pretende la prisión permanente revisable

y hoy nos encontramos y voy terminando ya

ante este debate fruto de una iniciativa presentada en el congreso de los diputados

desde el año dos mil quince hasta nuestros tiempos no ha sido objeto de polémica ni de controversia más bien al contrario

ha reconfortado en buena medida a una parte importante de la población pero nos encontramos con una iniciativa del partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados que pretende esta figura ha iniciado la derogación su tramitación es un proceso largo el congreso de los diputados se debe sustanciar todavía una serie de hitos en su tramitación

queremos hoy aquí es solicitar al resto de formaciones de esta cámara singularmente al partido nacionalista vasco y al partido socialista

y queremos solicitar una rectificación fruto de una reflexión si es una medida que existe en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno

si es una medida que cuenta con un aval mayoritario social si es una medida que cuenta también con el aval jurídico

importantes expertos si es una medida que lo que pretende es garantizar el mandato constitucional de posibilidad de reinserción

de manera efectiva pero lo que pretende también es dar una respuesta penal contundente y dura

es una medida buena y es una herramienta positiva para ordenar nuestra sociedad y en este caso para dar una respuesta penal como les digo a crímenes de especial gravedad y trascendencia por eso me permito solicitarles y a través de esta proposición no de ley es lo que pretendemos

allí donde tiene que tomar la decisión para que cuando toque

no sea derogada muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

en que se reitere en esta cámara en la cual no reside la

en esta materia un debate que se ha producido en el órgano competente que es el congreso de los diputados porque pedir la influencia a nuestros grupos no es necesario que el parlamento vasco tome

acuerdo entonces yo creo que hoy habrá poca novedad en los discursos o en el posicionamiento que los grupos de esta cámara vamos a realizar yo lo que no sé si voy a ser breve lo que sí le voy a seguir es el consejo de debatir con serenidad porque la cámara no es para dar espectáculos nosotros lo que creemos el grupo socialista

y reconocemos que cada cual puede proponer un modelo y el que nos plantea a debate el partido popular pues no es nuestro modelo de política penitenciaria es un modelo

de la prevención de la comisión de delitos graves ni redime el dolor que puedan sufrir las víctimas de los delitos más abominables que se puedan producir y que a todos nos remueve cabe otra interpretación que es la que hoy usted nos ha traído aquí pero no es la nuestra la nuestra es que es una medida

que llena cárceles pero que no atiende a las necesidades de justicia y de reparación que tienen las víctimas que no evita la comisión de los delitos usted ha evitado

delitos execrables ni favorece el arrepentimiento de los criminales y esa es la razón por la que nuestro grupo el grupo socialista va a votar en contra de su

en relación a las cuestiones penitenciarias se analizaron las distintas realidades legales de nuestro entorno democrático y expresamente desde el principio se vetaron

perpetua para todo tipo de delitos sin ningún tipo de excepción y a los socialistas nos pareció entonces y nos parece una decisión acertada fue a partir de ese descarte que se recoge en el artículo quince de la constitución cuando se redacta el artículo veinticinco punto dos y que lo voy a leer de forma íntegra por un motivo concreto que luego le diré

y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados

a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo de los que le recoge la constitución a excepción de los que se vean expresamente limitados

por el contenido del fallo condenatorio el sentido de la pena y la ley penitenciaria

tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad y se lo he querido leer entero porque al hacerlo yo creo que se ve la integridad de la intención que tuvo el constituyente

y la de la preservación de los derechos que tiene el penado y si la constitución prevé que un penado tenga derecho al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social es porque está pensando en una vida fuera de la cárcel para la gente que es penada

muchos incluso piensen que los criminales no merecen siquiera estos derechos pero nuestra constitución se los garantiza y la alternativa que nos presenta el partido popular hoy creemos que no no lo hace porque lo que propone bajo nuestro punto de vista es el encierro de personas entre las cuatro paredes de una celda

esto es una opción de política penitenciaria pero no es nuestra opción de política penitenciaria la nuestra no es que el código penal sirva para almacenar personas por tanto este es el primer argumento para rechazar esta proposición

nuestra interpretación del modelo penitenciario coincide con la que realizaron los constituyentes de la carta magna a esto le tenemos que sumar la cuestión de la eficacia para evitar los delitos

en las democracias incluso la pena más grave existente que es la pena de muerte

para evitar el terrorismo yihadista sobre el que se mantiene el riesgo en nuestro entorno porque a personas dispuestas a matarse así mismo de poco les va a disuadir la posibilidad de una condena a muerte y citando algo lamentablemente

un endurecimiento expreso de las condenas en caso de agresión machista y eso no está evitando ni evita la luctuosa estadística que lamentamos aquí de forma unánime por eso nos hemos empeñado y en eso hemos venido coincidiendo todas y todos y es la línea de trabajo que queremos seguir

antes de que una mujer acabe asesinada por tanto tampoco el endurecimiento de las penas puede ser sostenido desde el punto de vista de garantía de seguridad

está muy por encima de la media del resto de países europeos por lo que no quita también es cierto que tengamos nosotros una media de cumplimiento

el dato objetivo que tenemos es que la tasa delictiva ha disminuido de forma notoria antes de la entrada en vigor de la prisión permanente revisable en el año dos mil quince y también

reconocemos que la percepción de seguridad puede ser otra por parte de la ciudadanía por el impacto público que tienen algunos de estos crímenes que a todos nos conmueven a ustedes y a todos pero esa percepción

en caliente sino que debe de combatirse desde la información la reflexión y la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía por otro lado y en cuanto a la cuestión de la reincidencia es probablemente el asunto que más dudas puede suscitar

alguien que haya cometido un crimen al salir de la cárcel pues pueda volver a cometer delitos graves bueno

en la actualidad entre treinta y cuarenta años de prisión y salvo quienes pertenecen algún tipo de banda organizada la reincidencia es ínfima usted ha mencionado cuatro casos a lo largo de la historia seguramente si hubiese encontrado veintitrés nos los hubiese dicho usted lo sabe quienes suelen reincidir

esta figura de prisión permanente nosotros lo que creemos es que de lo que se trata

que la inmensa mayoría de los casos da buenos resultados casualmente ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en comisión a responsables de política penitenciaria y nos dijeron o nos comentaron cómo la apuesta que ellos han hecho y el refuerzo de las políticas penitenciarias basadas en la reeducación y la reinserción del penado

una disminución de la tasa de reincidencia por debajo de la que tenían en este momento en el estado son datos objetivos y contrastables que pudimos y que usted también puede consultar un esfuerzo educador y de intervención social que debe también tenerse en cuenta antes y eso nos lo dicen todos los expertos antes de la comisión de los delitos un objetivo que es fundamental

persigue por ejemplo el ayuntamiento de bilbao con la aprobación del pacto de seguridad que se ha respaldado de forma unánime por todas las formaciones políticas esa es una forma de trabajar

la última cuestión a la que me quiero referir y también desde la serenidad es la del punto de vista de las víctimas partamos de que para ellas jamás habrá consuelo posible ni castigo suficiente que pueda resarcir su dolor

no puede compensarse de ninguna manera lo que las víctimas requieren es justicia que haya un castigo y que sea acorde al daño causado

adulta es como no decirles nada porque todo les parecerá insuficiente

pero sí creemos que desde euskadi tenemos algo que aportar a este debate aquí hemos sufrido un crimen organizado que se dedicaba a aniquilar personas y aniquilar voluntades políticas y aquí se ha acabado con ese crimen sin la necesidad de la prisión permanente y si algo hemos tenido aquí es unas víctimas exigentes extraordinariamente exigentes con los poderes públicos pero que no se han llevado sus exigencias a donde se quieren llevar ahora y las víctimas también hay que recordarlo y usted lo ha hecho son distintas y con distintas opiniones

la vigente legalidad penitenciaria y lo que ellas piden es que no haya saltos en la ley

de penados para los socialistas esta actitud ha sido esencial también para poder acabar con ese crimen organizado porque ha habido que ver cosas muy dolorosas

mientras nos mataban a nosotros mismos jamás

se nos habría ocurrido deslizar la más mínima sospecha de responsabilidad ni arrojar la memoria de un asesinado y sus familiares sobre otra fuerza democrática o sobre un gobierno

además de perder a compañeros creemos que la actitud responsable que tuvimos entonces para gestionar el dolor y la reparación de las víctimas es la misma que debemos mantener hoy ante otro tipo de crímenes por tanto

que hay otras opiniones sobre el castigo y usted lo ha explicado muy bien los socialistas vamos a votar en contra de la proposición que usted nos trae aquí porque creemos que

ni nos va a hacer más seguros ni nos va a hacer un mejor país

presoaldi iraunkorra cuando hablamos de prisión permanente revisable señor sémper no tenemos por qué utilizar subterfugios podemos hablar de prisión

el debate sosegado no tiene por qué ocultarse detrás de subterfugios como palabras huecas como revisable

no la acepta porque no es necesaria porque no tiene capacidad de evitar los crímenes

porque es contraria a lo que establece la constitución porque es contraria a los derechos humanos básicos y porque rompe los valores humanistas que inspiran nuestra sociedad

todas y cada una de estas cuestiones usted ha comenzado dando datos de países que tienen la prisión perpetua se le ha olvidado mencionar en particularidades fundamentales que nos hacen diferentes a los demás fíjese en españa el cumplimiento íntegro de las penas

conlleven entre treinta y cuarenta años de prisión entre treinta y cuarenta años efectivos de prisión

puede establecerse la libertad vigilada durante otros diez años y no existe

en otros países donde existe cadena perpetua o similares el periodo

en francia en alemania quince gran bretaña doce en suecia diez esos países no tienen nada que ver con nuestro país ni con la prisión permanente revisable que ustedes proponen y que ustedes implantaron no tiene nada que ver

el control judicial conlleva a que no exista un riesgo grave de reincidencia y a que el adecuado castigo esté garantizado por lo tanto no es necesaria en ningún caso

y hay que decirlo la prisión permanente revisable o la prisión perpetua no impide los crímenes no tiene esa capacidad de impedir los crímenes que es lo que desea la sociedad

lleva tres años en vigor en españa y no ha impedido ninguno de los crímenes y no citaré nombres ni tampoco describiré los asesinatos

o la alarma mediática no tiene capacidad de evitar que existan potenciales criminales porque en ninguna

por lo tanto establecer penas mayores no garantiza nada al contrario multitud de expertas en derecho penal y de criminalistas

que el potencial criminal valora mucho más la certeza de que vaya a ser condenado que la gravedad de la pena a la que vaya a ser sometido

no funciona bien y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es una reforma de la justicia que la prisión permanente revisable tampoco va a garantizar evidentemente

para proteger con medidas de protección eficaces para mujeres o para niños y niñas no lo va a hacer no va a ir por ahí y tampoco va a permitir por ejemplo que existan sistemas de transmisión de información más agiles y rápidos para que se crucen los datos

por dónde va entonces la prisión permanente revisable pues va en no respetar los derechos humanos básicos usted ha dicho

no lo cumple esta prisión permanente revisable el convenio europeo de derechos humanos dice que tendría que revisarse la condena antes de veinticinco años y que tendría que haber programas penitenciarios de resocialización bien la prisión permanente revisable se puede revisar a los veinticinco a los veintiocho a los treinta o a los treinta y cinco

falso porque no establece un horizonte determinado y cuando no hay certeza de cuando te van a revisar la pena lo que se produce es la destrucción psicológica de la persona porque no sabe cuánto tiempo va a estar no sabe cuánto tiempo va a estar y cuándo podrá salir entonces cuando usted dice

de que obtengan capacitaciones de reinserción es precisamente lo contrario cuando no hay certeza de cuándo vas a salir

y lo que haces es que no tenga ninguna posibilidad de reinsertarse ninguna posibilidad pero ojo que es que nuestro sistema tampoco tiene medios ahora mismo para reinsertar

no hay unos programas claros de reinserción como he dicho esta pena no va a asegurar en absoluto que mejoren nuestro sistema de justicia ni siquiera en el ámbito de la reinserción ni siquiera en ese ámbito pero como digo no buscar impartir justicia

es lo peor que puede tener la prisión permanente revisable cuando se sustancia

en una petición de venganza de venganza no de justicia sino de venganza eso nos está

mucho más peligrosos y violentos como estados unidos que tiene cadena perpetua y tiene además pena de muerte y no son más seguros

lo que quiere la gente es vivir en un país seguro y españa y euskadi son países seguros son uno de los países más seguros del mundo españa y euskadi son uno de los países más seguros del mundo y lo que vamos a conseguir es un retroceso de doscientos cincuenta años porque fíjese

abolió la cadena perpetua textualmente para permitir a la legislación española ocupar un puesto de honor entre las más humanitarias eso vamos a perder una vez más

implicaba un indulto a los treinta años que ahora sobrepasamos

que cualquier pena que exceda de lo necesario para prevenir futuros delitos es

democrática y humanista avanzada esta renuncia a los valores de humanizar el sistema penal y penitenciario que tienen todos los países europeos

sí que lo tienen hacen que en lugar de que nuestra sociedad sea más segura y humana vayamos a una sociedad del ojo por ojo

de insultos racistas en las redes de acoso colectivo a menores que son hijos de presuntas culpables eso es lo que hemos visto en los últimos meses y estamos abandonando una sociedad segura para ir a la ley de la selva para ir a una sociedad inhumana con una pena innecesaria e ineficaz que nos lleva a la barbarie y a la ley de la selva y nuestro grupo
no quiere eso señor sémper eskerrik asko becerra jauna

yo hay una frase que he leído que me parece que es muy importante y además la dice una persona que tuvo responsabilidades en instituciones penitenciarias y que no es de euskal herria bildu y que no es de la izquierda abertzale

y dijo es difícil imaginar un castigo más cruel que la cadena perpetua que es condenar a alguien a vivir sin horizonte

sin futuro para muchas personas es un castigo más

que algo conocía de cómo funcionaban las cárceles de cómo se cumplían y cuando lo dijo acababa

la cadena perpetua estaba en el código penal español lo ha dicho el compañero de podemos ha hablado del código de mil novecientos veintiocho ese código

y de allí salió la cadena perpetua y cuándo ha vuelto con la mayoría absoluta de mariano rajoy

están ahí y es un muy mal eufemismo llamarle a esto prisión permanente revisable porque no es verdad y ustedes le llaman así porque no se han atrevido a ponerle el nombre real y le han puesto un nombre para que pensemos que efectivamente es bueno y es acorde y le han puesto este nombre y algo de vergüenza les tiene que dar

ni tan siquiera lo que quieren y han tenido que inventarse un nombre para lo que en realidad no deja de ser la cadena perpetua y había ya una ley en españa en el dos mil tres

de prisión la pena máxima ya estaba establecida en cuarenta años de prisión mire y no hay que hacer una gran suma kristolako batuketa ez da egin behar

le han hablado mis compañeros que han hablado antes que yo de una serie

dos cosas usted ha dicho que no compromete

inhumanas y degradantes y que hay resoluciones judiciales que avalan esta cuestión

por lo menos en dos sentencias en una contra el reino unido

ha puesto de manifiesto que la cadena perpetua así como las penas de larga duración en determinadas circunstancias

de derechos humanos particularmente acerca de las penas de larga duración

preocupación cuando no existe ningún espíritu de poder beneficiarse de medidas como por ejemplo la libertad condicional es decir

lo dice europa lo dice europa ya sé que a ustedes lo que dice europa les importa no mucho pero lo dice no dice lo que usted dice dice otras cosas diferentes

ha hablado de estas cuestiones y también ha dicho que no dicen ustedes que no tienen ningún principio ningún reparo a los principios penales pues sí los tiene

porque los principios que deben inspirar el código penal las leyes tienen que ser otros valores

y los que inspiran esta ley no son esos por eso yo le decía antes que es muy importante hacer las leyes para ver qué sociedad queremos y cómo la queremos hacer y los principios inspiradores no son estos en el estado español las leyes tienen un carácter esencialmente punitivo esencialmente

en materia penal están hechas con el populismo punitivo y qué pasa pues que plantean cuestiones que tienen más valores simbólicos

y que entonces el debate es otro y no se puede legislar desde ahí y no se puede legislar con esos parámetros

galdera la verdad es que la pregunta es y la que nos deberíamos hacer cuando hablamos de estas cosas si como sociedad estamos dispuestas a asumir una medida de este calibre una medida que es cruel que se ha demostrado

que es ineficaz que es innecesaria en vez de hacer lo que tendríamos que hacer

de todo tipo educativos de prevención medidas de todo tipo de características para reducir eficazmente los delitos y para hacer las cosas de otra manera y nuestra respuesta es a favor de eso nuestra respuesta es a favor de eso y como es a favor de eso

gai honekiko la cadena perpetua no hace a una sociedad más segura

no la hace mejor porque si la venganza y la justicia se confunden no estamos haciendo las cosas mejor ni para erradicar delitos

a la proposición no de ley urgente del grupo popular pero me imagino que por las iniciativas llevadas a cabo con nuestro partido en el congreso de los diputados no tendrán ninguna duda los proponentes

un no y un no además rotundo a la cadena perpetua introducida en la legislación penal en dos mil quince por el partido popular

la incorporación de la cadena perpetua revisable en el código penal supone la modificación más regresiva de la legislación penal en las últimas décadas

retrocediendo un siglo en materia de derecho penal atzerapen handia da

el pnv ya se posicionó en contra en las cortes generales al igual que todo el arco parlamentario y presentamos junto a diputados del resto de grupos un recurso de inconstitucionalidad en junio

y también indirectamente la cadena perpetua al exigir que las penas estén orientadas a la reeducación

que ha leído ella entendemos que esta pena choca directamente con los principios de reeducación y reinserción social del recluso además al ser indeterminada

principio que entendemos básico en un estado de derecho en su vertiente de seguridad jurídica y no es proporcional salvo desde una visión propia de la ley del talión de la justicia incompatible en un estado de derecho y conculca también al derecho a la dignidad de las personas

pero la pregunta es si era necesaria esta medida con el alto coste para los derechos humanos que supone podríamos pensar

para la adopción de esta medida pero nada más lejos de la realidad según el anuario estadístico del ministerio de interior las memorias policiales judiciales y fiscales la cifra de delitos más graves no deja de disminuir de hecho españa se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo pero por contra cuenta con una de las mayores tasas de población reclusa ayer se nos decía

y se encuentra también en los niveles más elevados de cumplimiento de las condenas

son de veintiuno coma nueve meses más del doble que los nueve coma ocho meses que se cumplen en los cuarenta y siete países analizados por ejemplo

y alemania ocho coma dos esto demuestra que el código penal español era uno de los más duros de europa y esto ocurre como decía la señora goirizelaia desde la reforma del dos mil tres

reservadas para los delitos más graves hasta cuarenta años de cumplimiento efectivo por lo tanto nos parece incongruente este rigor punitivo excesivo

según el cis en julio del dos mil quince fecha en la que entra en vigor el nuevo código penal las preocupaciones de la ciudadanía nada tenían que ver con las problemáticas generalmente asociadas a esta medida inseguridad ciudadana terrorismo etcétera tampoco a día de hoy si atendemos al barómetro elaborado

de acuerdo con estos datos del cis la sociedad española estaba y está más interesada en que se tomen medidas encaminadas a la reducción del desempleo y la corrupción

en concreto la preocupación por la inseguridad era uno de los tres principales problemas únicamente para el dos coma siete por ciento de la población por lo tanto señor sémper

era una medida reclamada por los expertos ni el consejo de la abogacía ni la doctrina mayoritaria criminalista

ni la policía judicial ni el personal de instituciones penitenciarias incluso el tribunal supremo ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad

se da incluso la circunstancia de que el legislador no justifica las razones que le han llevado incorporar

dicha falta de motivación tanto por el consejo general del poder judicial como por el consejo de estado se habla simplemente de nuevas demandas sociales y la necesidad de fortalecer la confianza

al albur de circunstancias por muy execrables que sean que ocurren en un determinado momento y lo que más populista pueda ser

que ya contempla cuarenta años de prisión que pueden ser perfectamente efectivos qué se busca con esto justicia o venganza entendemos que el legislador tiene que abstraerse de la venganza y buscar justicia las víctimas de estos crímenes horrendos

estas deben contar no solo con ayudas estatales sino con una protección especial

pero no deben intervenir en la labor legislativa punitiva salvo que lo que se busque sea venganza y no la justicia rehabilitadora que debe inspirar un sistema penal democrático

puede que ni siquiera la de muerte será consuelo suficiente para los padres de un menor asesinado por tanto ninguna pena puede ser elaborada con tal fin

más o menos duras sino adaptando el servicio público a las necesidades de la ciudadanía atendiendo a las demandas de jueces y fiscales que están amenazando huelga porque

se ha argumentado también que es una pena existente en muchos ordenamientos democráticos y es cierto aunque solo desde el punto de vista meramente

es cierto que hay países que lo recogen otros que no lo recogen como portugal escocia croacia que no tienen la cadena perpetua pero este argumento parte en primer lugar de un desconocimiento histórico importante que es que la cadena perpetua en la mayor parte de estos países europeos es un residuo histórico

de la pena de muerte para el castigo de los delitos más graves a diferencia de españa donde la cadena perpetua se abolió incluso antes de la pena de muerte

la cadena perpetua española es la más dura de europa llevando los plazos de revisión más allá de los veinticinco años que el tribunal europeo considera un límite razonable un país

como españa con un código penal entre los más duros de europa no creemos que necesite medidas de este tipo

respecto a su posible constitucionalidad o no la pena de prisión permanente revisable debiera ser derogada de nuestra legislación penal por ser inhumana y totalmente innecesaria inoportuna e ineficaz y consecuente a ello y con gran convicción

y así como hablaba el señor sémper de que aquí se ha tratado con cierto retraso les instamos a que en el congreso no se produzcan estos retrasos

como desgraciadamente hemos podido comprobar hace escasas semanas con esta pena en vigor la misma

pero sí que puede poner en peligro los valores básicos de la democracia moderna

el concepto de justicia entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad

del sistema penal de un estado que se denomina democrático y de derecho que debe sustentarse en una serie de valores humanos que deben alcanzar tanto a las víctimas como a los infractores

por eso en definitiva se trata de una sanción desde nuestro punto de vista desproporcionada inhumana indeterminada y contraria

ejemplo de la ineficacia de las políticas de mano dura sino que apuesta

con la resocialización y reinserción como objetivo y por todas estas razones jurídicas de eficacia político criminal sociales e incluso morales expuestas votaremos en contra

empezando por el portavoz del partido nacionalista vasco yo creo que conviene también que a la hora de

acerquen a la realidad usted ha hablado de ley del talión y probablemente pueda parecer una cuestión menor pero me parece relevante todos sabemos lo que es la ley del talión

obviamente no estamos hablando aquí en esos términos lo digo porque conviene rebajar el ímpetu para hablar

la prisión permanente revisable que lleva aprobada desde el año dos mil quince por lo tanto nadie está hablando de que

que es lo que les estamos pidiendo a través de esta iniciativa que reconsideren que demos una oportunidad un tiempo a esta figura jurídica para ver cómo funciona ya les digo hasta

con la sierra eléctrica con un cuchillo y drogándoles previamente el que ha sido condenado a través de la prisión permanente revisable por cierto cómo prevenimos que un individuo ponga en marcha una sierra radial

cómo previene eso es materialmente imposible de prevenir si hablamos con franqueza

y si seguimos hablando con franqueza probablemente ese tipo no tenga reinserción posible por su actitud durante el juicio

y por su actitud posterior ampliamente conocido para cualquiera que se quiera acercar a los informes

no tenga reinserción posible probablemente tengamos que aceptar que hay individuos que hay hombres y mujeres

porque no tienen ni esa capacidad de reinserción no solo porque sus delitos hayan sido extraordinariamente graves y execrables

o nos olvidamos también de esto es verdad que la orientación de las penas

que crece en función de la gravedad del delito y que algunas de las sociedades insisto de nuestro entorno han decidido utilizar esta herramienta miren

que no existe una sensación de inseguridad generalizada en nuestro país es verdad vivimos en un país afortunadamente vivimos en un país en términos generales seguro sobre todo en términos comparados pero esto no es por

es porque funciona nuestra policía porque funciona la guardia civil es porque funciona la ertzaintza

penal es porque hay un contexto cultural y social que funciona

hay gente que es capaz de cometer delitos y atrocidades como los que todos tenemos en la cabeza y que es gente que no hay posibilidad alguna de ser reinsertada en sociedad

lo que se trata no es de prevenir el delito que es materialmente imposible de prevenir es como si alguien pretendiera decir

como no evita los accidentes mortales al año hay que acabar con el código de circulación o que es inservible esto no es la naturaleza de la respuesta punitiva de un estado de derecho tiene

de prevención de disuasión pero no es la orientación fundamental de un código penal en ninguna de nuestras sociedades modernas tiene fundamentalmente una respuesta retributiva punitiva ante un daño ocasional y oiga en italia son veintiséis años para poderse revisar

veinte en grecia son veinte no lo ha corregido el señor tsipras son veinte años

de nuestro ámbito geográfico esta la orquilla entre veintiuno y treinta cómo se puede decir señor becerra una intervención serena es la ley de la selva

la ley de la selva dicho de otra manera si el cumplimiento integro de penas que habría mucho que debatir sobre esto porque evidentemente no por matar a un niño de cinco años por asesinarle te cae cuarenta años de pena ojo ni tienes por qué cumplir íntegramente la pena ojo

y aunque no exista una respuesta penal adecuada al asesinato de un niño de ocho años evidentemente

contundente pero nadie te garantiza que vaya a pasar el resto de tu vida en la cárcel ni mucho menos

y nadie te garantiza que no puedas salir con un permiso y reincidir es que

la ley de la selva la que impera en esos países que acabo de numerar es que no es cierto es que no es cierto que sea contrario a la constitución española o en todo caso hay un recurso ante el tribunal que habrá que esperar ustedes han legislado en caliente

es que no es contraria a los derechos humanos es que no es contraria es falso porque el tribunal europeo de los derechos humanos se ha pronunciado expresamente sobre esta tribuna es que la corte penal internacional también

que habla además de la revisión a partir de los veinticinco años como fecha tope tolerable es lo que dice oiga podemos discrepar sobre idoneidad pero no sobre los datos objetivos

señora presidenta miren la señora goirizelaia preguntaba

verdad no de hoy sino permanente es qué modelo y valores queremos por sociedad

convivir a diferentes en un mismo espacio público y luego hay aspectos concretos como la sanción penal la respuesta penal ante crímenes y la señora goirizelaia ha hecho una segunda pregunta de si es asumible

la prisión permanente revisable mire nosotros creemos en la reinserción creemos en la posibilidad de ser reinsertado un preso que haya cometido un delito por cruel

porque lo dice la constitución fundamentalmente y porque está en nuestro ánimo en nuestra forma de entender la vida y entender el mundo

y lo que queremos es que a quien ha cometido crímenes execrables

extraordinariamente dura porque creemos también que el código penal tiene esa función y debe de responder con firmeza y con dureza a quien es capaz de cometer crímenes execrables
lo queremos firmemente y creemos que hay gente que no se puede reinsertar amaitu mesedez sémper jauna y yo estoy convencido y estamos absolutamente convencidos que un tipo

de asesinar a sus hijos de cuatro y nueve años utilizando un cuchillo y drogándoles previamente ese tipo

debatir en caliente y eso es seguramente lo que hicieron algunos en el congreso de los diputados por algún interés

señor sémper no deberíamos de estar hablando de esto porque esto teníamos

una cámara perfectamente válida para su discusión pero ustedes por algo y sabe muy bien qué es lo que hay detrás no solo a esta cámara a todas las cámaras autonómicas y a todos los ayuntamientos ustedes sabrán por qué nosotros lo tenemos bastante claro pero usted tiene una cierta incongruencia porque me dice sino tiene reinserción

no tiene reinserción no tiene que salir eso es lo que ha dicho usted aquí sabe cómo se llama eso cadena

no es posible no es posible de acuerdo y usted y eso es lo que realmente están defendiendo es decir dice cosas y que no son correctas nosotros

innecesaria porque nuestro código penal

a cuarenta años ya pasó de treinta a cuarenta el cumplimento para los delitos más graves

no todo tiene cumplimiento integro como no todo es prisión permanente revisable verdad pero es que con la anterior legislación eso significa

sentencias abultadas el máximo cumplimiento que establece nuestro código penal son cuarenta eso significa que el tercer grado no se puede alcanzar antes de haber cumplido los treinta y dos años

nunca antes de haber cumplido los treinta y cinco eso antes de la reforma del dos mil quince y usted sabe perfectamente aunque quiera coger ejemplos que

de la revisión en los países de nuestro entorno europeo aquellos a los que normalmente nos queremos parecer pues está muy por debajo y no es cierto que el reino unido tenga un promedio de veinte lo tiene en catorce la revisión como francia lo tiene en veinte y alemania

no en los veinticinco ó treinta y cinco que se propone y usted sabe también que cuando se hizo la reforma del dos mil quince no había

de europa en concreto el número de asesinatos anuales que ha descendido en un treinta por ciento las últimas tres décadas habla de que tenemos una tasa de cero coma ochenta y cinco

de homicidios voluntarios esta tasa es un sesenta y cinco por ciento inferior a la media europea que está

esta en menos de una quinta parte de la de estados unidos un cuatro coma setenta y cinco con cadena perpetua y pena de muerte o una fracción de lo que sucede ya en otros países que nada tienen que ver con la tipología de su código penal como es la latinoamérica con un veinticinco

objetivos que les avalen en esta modificación y para nosotros y lo que es fundamental contra el principio de reinserción y reeducación que creemos que garantiza la constitución española y que además la creemos y la compartimos y defendemos

pues con actuaciones previas a la comisión del delito porque la prisión permanente revisable no va a evitar que

va a ser posterior no lo cogerá para otros vale queremos evitar que eso suceda y eso no se consigue con la pena permanente con ninguna pena se consigue

socialmente antes y reforzar determinadas políticas de acuerdo y por tanto si realmente usted es verdad que ha cerrado su intervención diciendo que usted cree en la reinserción y en la reeducación lo que deberían de hacer y apostar desde el gobierno que ustedes ahora dirigen es una apuesta clara por la resocialización y la reeducación en las cárceles en la institución

políticas más efectivas en ese tema por tanto nosotros lo que creemos es que tenemos que seguir aplicando la política penitenciaria

y es el modelo que queremos defender su propuesta creemos que va en el sentido contrario y por tanto tanto en este parlamento como en el resto de parlamentos autonómicos o en aquellas entidades locales en las que ustedes quieran llevar este tema nuestro voto siempre será el mismo no

ha dicho que el objetivo de la pena tiene que ser garantizar un adecuado castigo y evitar la reincidencia en eso coincidimos será en lo único no ha dado ningún dato excepto cuatro ejemplos que ha puesto de reincidentes no ha dado ningún dato de cuáles son las tasas de reincidencia en españa y en otros países no lo ha dado ha dado ejemplos de cuatro personas que en un permiso

yo lo que le he dicho es que esta pena es innecesaria porque

y la posibilidad de reincidencia con el sistema judicial que tenemos es mínima

existe un control judicial en algunas ocasiones en alguna ocasión puede suceder que no se cumpla cuatro

es que se haga justicia es que se haga justicia cuando suceden estas cosas que vemos en los periódicos en los medios de comunicación lo que la gente dice es que se haga justicia

si usted quiere que haya justicia y que no haya venganza y estoy seguro de que lo quiere

garantice su gobierno que haya un mejor sistema de justicia si queremos

con orden de alejamiento no mate a sus hijos sea con una radial o sea como sea garanticemos

garanticemos que se cumpla el sistema de justicia

que todas las mujeres y niños y niñas que están sometidos a amenazas estén seguros no lo está garantizando porque el sistema de justicia no está funcionando bien no está poniendo los medios adecuados

trabajen en ese sentido y si queremos asegurar que las víctimas de delitos graves se vean satisfechas se vean arropadas por la sociedad lo que no podemos hacer es poner una prisión permanente revisable solo para ocho delitos

entre esos delitos no están los kamikazes de tráfico no están los torturadores no están las personas que secuestran y matan personas no están los traficantes de drogas tampoco están hay muchos delitos que ahora mismo no están tratados igual que los que están sometidos a la prisión permanente revisable estanos haciendo víctimas de primero y de segundo grado porque a quien le han matado un hijo atropellado

tiene los mismos sentimiento que a quien le han matado un hijo con una sierra radial y no quiero ponerme truculento pero es que esto es así esto es así señor sémper

ustedes sí están legislando en caliente con determinados delitos concretos y no con otros

y mire no lo he citado al principio pero la señora castelo lo ha dejado caer

si he dicho al principio que traer este debate es doblemente erróneo es porque en euskadi hemos tenido décadas de sufrimiento con crímenes crueles y horrendos horrendos y sin embargo esta sociedad

el odio y la sed de venganza sobre la base de la firmeza democrática y sobre la base del compromiso ético

esta sociedad la sociedad vasca conoce el camino de la justicia y sabe que para coger ese camino ni valen atajos

que ya se está demostrando con el tiempo que no es no es la solución que necesita este país y por lo tanto yo le animaría ya no solamente a que se planteen la prisión permanente revisable sino que directamente no sometan a votación esta propuesta suya porque

me he encontrado que los juristas los ex jueces magistrados del tribunal supremo personas que han estado trabajando en el tribunal constitucional

con argumentos técnicos con argumentos jurídicos nos explican por qué y me he encontrado a personas

o laura matamoros o personas de este tipo que se posicionan a favor con unos argumentos técnicos de tal calibre que si yo fuera así lo que quisiera es que le maten y lo mejor es tal pero como no se puede cadena perpetua es decir eso es

no queremos no queremos que esos valores en esos términos se reflejen en las leyes porque no queremos hacer una sociedad así

no me haga un falso dilema no me diga que tengo elegir entre derechos humanos

que tengo que elegir en este debate entre una cosa y otra porque no es incompatible la reinserción con la seguridad con los derechos no es incompatible

y esta ley no lo hace compatible hace todo lo contrario

una ley más dura yo no creo que nos vaya proteger en absoluto ni en la racionalidad ni en los trastornos de personalidad ni de ninguna

es que ya sabemos que eso no va a pasar pero ese no es el debate el debate es

dice estoy de acuerdo con la reinserción pues disimula usted y su partido cómo disimulan ustedes

alguien pide beneficios penitenciarios con las leyes en vigor que además dicen lo de la reinserción cada vez que alguien plantea que quiere salir aplicando la ley cada vez que pide las directrices de instituciones penitenciarias

en contra de cualquier pronóstico de reinserción

incluso aunque se haga un balance y se diga que algunas personas que solicitan eso tienen un pronóstico de reiteración delictiva cero pero el pronóstico de reinserción no es bueno y ustedes dicen que no

póngalo en práctica ya le estoy hablando de casos muy concretos que usted lo sabe

muchas cosas hay una cosa mire cuando habla usted y compara con las penas en otros países claro pero es que hay una cuestión muy clara en otros países por cierto los datos que ha dado no son reales se los han corregido ya de algunos países y el tiempo que dura

en este caso la pena que se pone y no se olvide que me he leído bien los artículos

es indeterminada porque no se dice cuándo se dice a partir de pero en los demás países europeos se dice en tantos años

aquí se dice a partir de y de quién depende el a partir de pues seguramente

que tienen un concepto de reinserción no a favor del reo ni de la persona que está cumpliendo por eso planteaba yo que el otro debate tenía que ver con la

eskerrik asko beno en primer lugar hablaba de legislar en caliente

en la que el partido popular no planteó a pesar del endurecimiento

el endurecimiento también para la obtención de beneficios penitenciarios no se planteó le voy a corregir decía que desde dos mil once defendían su inclusión en el código penal no fue en el dos mil once fue en el dos mil nueve en el dos mil nueve

el partido popular en sus enmiendas hablaba de prisión perpetua revisable un poco más claro que ahora y es más el propio señor rajoy hoy presidente del gobierno dijo que no hay que tener miedo a la cadena perpetua si es revisable por lo tanto

a partir del dos mil nueve cuando el partido popular empezó con este tema pero por qué usted dice que el compromiso o la estrategia electoral parte del dos mil once pues no le voy a recordar cuáles fueron las circunstancias que se produjeron en ese momento yo creo que todos somos conscientes de dos crímenes

como lugar el compromiso del partido popular en esta estrategia electoral estrategia electoral que hoy quiere poner seguir manteniendo en este parlamento

con iniciativas en distintos parlamentos autonómicos juntas generales y ayuntamientos y bueno el bochornoso pleno del congreso de los diputados que se ha mencionado anteriormente yo sí que le quiero poner claro que la legislación penal desde nuestro punto de vista no debe utilizarse electoralmente

se lo he dicho dos veces en castellano y en euskera el partido nacionalista vasco independientemente de lo que diga el tribunal constitucional

totalmente innecesaria inoportuna e ineficaz hablaba del tribunal europeo de derechos humanos

al estado español le suele dar detrás de las orejas continuamente doctrina parot caso atutxa caso portu sarasola etcétera etcétera pero como le decía la señora jone goirizelaia

causaría una despersonalización de tal naturaleza que contravendría los artículos siete y trece de dicho convenio y también se ha pronunciado acerca de la vulneración del artículo cinco punto uno en aquellos supuestos en los que a pesar de la previsión de revisión como es el caso

indeterminadas violando la finalidad resocializadora también el comité europeo contra la tortura ya que hacía referencia

supone graves inconvenientes para la efectiva reincorporación del penado a la sociedad y el consejo de europa un poco antes en el setenta y seis reconoce que la ejecución de penas de larga duración

y su entorno no contribuyendo por tanto a la reinserción de los mismos por tanto aquí enfrentamos el fin resocializador y

al que usted decía que es legítimo el fin retributivo de las penas decía que cómo prevenir ponía un ejemplo un poco

fue parlamentario además dice que esto no se aprobó para prevenir la prisión permanente revisable no se aprobó para prevenir todo lo contrario está para castigar a quien los comete

la venganza la retribución la neutralización y la intimidación general y en definitiva la mano dura

al que usted hacía referencia y también como le decíamos antes entendemos que no es una manera de proteger a la sociedad no protege

son los medios para la justicia es la prevención del delito y es el acompañamiento de las víctimas hasta que lo necesitan estamos en el siglo veintiuno no en el diecinueve finalmente con este

viendo un programa de euskal telebista había un tertuliano afín al partido popular que decía qué gana el pnv con esta iniciativa qué interés puede tener

tendencia ideológica y por sus manifestaciones es más yo le añadiría qué gana el pnv con esta iniciativa qué interés puede tener con sus

pues mire le voy a contestar el pnv no gana nada lo que gana es nuestra sociedad somos un partido que defiende la orientación humanista de todo el sistema penal

internacionales en materia de derechos humanos y esta cadena perpetua que ustedes plantean es contraria a nuestros valores humanistas besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

me comprometo a ser rápida porque viendo las horas parecía que mi punto iba a quedarse para la tarde pero me alegro así que voy a intentar ser rápida y con el consenso que he encontrado pues esperemos que no tengamos ni que

seguir y unida a la interpelación que hice aquel día debo decir que hoy no me represento a mí misma que aquel día lo oí no me represento a mí misma quiero que quede bien claro por si quedaron dudas

y viven de la agricultura que trabajan y viven de la ganadería y que mayoritariamente comparten ese trabajo con sus parejas las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año

no como de manera personal la puesta en marcha de una ley no es algo personal es una voluntad política la puesta en marcha de una ley desde luego es la voluntad política en mayúsculas y ahora el gobierno tiene una oportunidad de oro para pasar de la teoría a la práctica

miles de mujeres que no pueden diferenciar entre el trabajo productivo y el reproductivo miles de mujeres que se tienen que hacer cargo de los cuidados de mayores de pequeños de caseríos de baserris de todo

con unos derechos laborales bastante más que dudosos miles de mujeres que tienen las veinticuatro horas para compatibilizar sus dos vidas la personal y la profesional dos vidas que se mezclan en una ser mujer en el sector primario significa la ausencia de derechos básicos

ser mujer en el sector primario supone llevar dos mochilas cargadas de problemas pero muchas veces no se pueden reivindicar y no se pueden reivindicar por miedo al futuro y a la situación esa sí personal

las mujeres en el sector primario no tienen en su mayoría una independencia económica

hay mujeres que queriendo romper con este tipo de relación laboral están impedidas porque hay leyes que impiden este hecho no son obstáculos teóricos no son obstáculos emocionales ni simbólicos son problemas reales que conocemos y que sabemos que existen cuando hablamos de una explotación familiar

en un monte no estamos hablando de una explotación posiblemente de una explotación de una de las partes y posiblemente de una explotación que está más reprimida que la otra

la falta de servicios sociales aquí la potencia de la desigualdad si me permiten se dice o se eleva a la máxima expresión ustedes quieren ser cómplices de eso yo no lo conozco muy de cerca y no quiero ser cómplice de esto

nos corresponde ofertar igualdad en derechos sociales y en derechos políticos

y dar la oportunidad para que puedan elegir elegir trabajar gestionar cuidar estudiar ocupar puestos de dirección ocupar asientos en estas cámaras también puestos sindicales

obligación hoy en esta cámara y me permitan que voy a retroceder al día ocho de marzo un día

me acuerdo que aquel día además a la bancada del pnv le pedí explícitamente

y bueno no me hicieron caso pero bueno es verdad que se perdió una oportunidad para mí una oportunidad histórica creo que dejaron pasar la oportunidad de decir alto y claro

desde luego para mí no fue un día de fiesta yo no vine a trabajar correcto estaba en la calle yo estaba de huelga fue un punto y seguido en la lucha feminista no fue un punto y aparte podríamos decir que fue algo polémico

y fue algo que dio mucho que pensar y concretamente en el sector primario en el sector rural porque ahí hacer una huelga significa que el mundo se para

una manifestación multitudinaria en la que tres tractores abrían la marcha una manifestación

y tres tractores que representaban a las mujeres trabajadoras del campo

representaban la unión a la tierra representaban el mantenimiento de esa cultura rural de esa cultura agraria representaban a los pueblos a las raíces

esos tres tractores del inicio de la marcha pusieron a las mujeres agricultoras y ganaderas a la cabeza de la lucha para que las que vengan que tienen que venir porque si no esto se despuebla lo tengan más fácil y tengan todos los derechos básicos garantizados beraz nik martxoaren zortzian

y me voy a quejar de una mujer no me suele gustar quejarme de una mujer pero en este caso me voy a quejar de una mujer de un partido y de una forma de hacer las cosas y me voy a quejar concretamente

del pnv me voy a quejar porque en política no hay que vender humo porque en política hay que ser humildes porque en este caso creo que ha pecado un poco de autocomplacencia si se puede decir así

presentó un informe desde su puesto de europarlamentaria en la onu un informe sobre la desigualdad de las mujeres rurales del mundo y efectivamente un informe que visibilizar los problemas que hay efectivamente de forma orgullosa mostraba en su mano y lo repitió en varias ocasiones lo bien que se estaba trabajando en el país vasco en el tema y lo innovadores que somos

podemos vender un estatuto cuatro punto cero podemos vender un estatuto

lo que no hacemos y en este caso es una ley que lleva casi tres años en el cajón una ley que está sin desarrollar

podemos vender algo que hacemos y esa ley podemos publicitarla pero si no le hemos puesto un euro si no la hemos presupuestado desde luego en cierta medida no estamos creyendo en ella o eso es lo que nosotros pensamos

que aunque había una ley efectivamente pero lleva tres años parada y que no tenía presupuesto solo faltó eso para redondear la entrevista en fin

más transparente un poco más humilde también nos beneficiaría a todos y a todas

voy a decir que las mujeres agrarias no se merecen esa forma de actuar concretamente no no se merecen se merecen justo lo contrario y voy a decir una cosa que a las mujeres

las mujeres agrarias lo tienen mucho más difícil que cualquier mujer en cualquier otro ámbito

en principio agradecer enormemente a los grupos su predisposición a llegar a un acuerdo

una proposición común pero nuestros tres puntos claros

que venían en la proposición inicial eran claros eran superconcisos pedíamos presupuesto pedíamos unos plazos

que la aplicación del estatuto no suponga más trabas burocráticas no suponga más trabas para el sector y no suponga maquillarlo para seguir cobrando ayudas en esto yo soy a primeras justo defienda lo contrario así que

en el primero hablamos otra vez de calendarios con plazos con objetivos y sobre todo que se cumplan en el segundo

el gobierno ya tiene ya tiene estructuras públicas para funcionar

lo pedíamos entonces lo pedimos ahora que no supongan más trabas que estén las mujeres en los órganos de dirección no suponga que se pare el día a día y el trabajo que tanto necesita el sector para seguir adelante que se garantice la participación en el desarrollo del estatuto es que no podemos verlo de otra manera si no participan las primeras afectadas no nos sirve de nada

yo no diría que es vender una imagen real estamos hablando de trasladar la realidad

y ya por último pues contarles a las mujeres lo que tienen contarles a las mujeres qué es este estatuto no tienen ni idea

no tienen ni idea o sea por favor una ley que casi ya tiene tres años necesitamos trasladarla y necesitamos convertirla en un derecho fundamental para ellas así que

rural las mujeres rurales constituyen la cuarta parte de la población mundial pero sufren desproporcionadamente exclusión violencia

la mortalidad maternal es mayor en las zonas rurales sufren desigualdades en las condiciones laborales no reconocimiento de la igualdad salarial subordinación

uso y el control de los bienes comunes necesarios para la producción de alimentos de los recursos productivos como la tierra el agua y el crédito así como

las mujeres tienen menos tierra de peor calidad y su tenencia es insegura globalmente solo poseen el dos por ciento de la tierra en muchos países sufren multitudes discriminaciones porque son mujeres pobres e indígenas viven en el campo y rara vez poseen tierras u otros bienes

en los trabajos en las cadenas alimentarias es fundamental reconocer las múltiples plurales diversas e interseccionales formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres que trabajan en el medio rural estas afirmaciones son de la vía campesina en euskadi aunque con características propias de nuestro territorio y contexto socioeconómico no escapamos a esa realidad mundial

último estudio cuantitativo sobre las mujeres en el mundo rural vasco un cuarenta y nueve por ciento de los municipios vascos son rurales y el cincuenta y nueve por ciento del territorio vasco es rural sin embargo del total de población vasca solo el cuatro coma siete por ciento reside en un medio rural y si

al igual que medios rurales de otros lugares del mundo nos encontramos con una tendencia a que la población esté masculinizada y envejecida

en el que las mujeres encuentran más dificultades que los hombres para desarrollar su vida cotidiana para habitar en el medio rural y también para vivir como agricultoras

tienen que enfrentar obstáculos y discriminaciones por motivos de género y además superar en el día a día más barreras que los medios urbanos para acceder y servicios veamos algunas pinceladas de esta realidad por ejemplo lo que tiene que ver con los cuidados con esa tarea imprescindible para la sostenibilidad de la vida

en el cuarenta y cinco por ciento de los hogares del medio rural se convive con personas dependientes

semanales al cuidado de niñas niños personas adultas mayores y dependientes las horas que dedican al trabajo doméstico son más del doble que los hombres las mujeres en el medio rural

cincuenta a la semana al trabajo a todo el trabajo el reconocido el no reconocido el remunerado el no remunerado

etcétera etcétera más de cincuenta horas semanales

realizan trabajos propiamente agrícolas o ganaderos el setenta por ciento llevan las cuentas de la explotación

suma y sigue las horas de trabajo de las mujeres son interminables queremos mencionar brevemente mujeres que no sean agricultoras pero que desarrollan su vida cotidiana en el medio rural se registra que un

es población joven que en numerosos casos llegan a esas pequeñas localidades

para el cuidado de las personas dependientes una realidad de la que todavía nos falta mucho por saber mujeres que presentan múltiples factores de riesgo de exclusión social por ser mujeres en una sociedad machista por su origen nacional o etnia en el medio rural y por ejercer una profesión poco reconocida a todos los niveles si bien a día de hoy se encuentran aprobadas varias herramientas legales a nivel estatal y autonómico dirigidas a la visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres

son necesarios compromisos claros y rotundos para sacar estos instrumentos del cajón

instrumentos al servicio del empoderamiento y de la lucha contra la desigualdad en el mundo rural sin recursos específicos y sin programas destinados a desarrollar el articulado de estas leyes no se producen cambios sustanciales que queremos generar en el mundo rural ante esta realidad el estatuto de las mujeres agrícolas es un hito

pero que corre el riesgo de quedar vacía como si no existiera debemos dotarla de contenidos concretos de medidas de actuaciones y cambios imprescindibles para que realmente

en el medio rural y en la vida de las mujeres este acuerdo al que hemos llegado puede ser una oportunidad para subsanar el silencio y la poca repercusión que este estatuto ha tenido en las políticas públicas

iniciar el camino que se debió poner en marcha inmediatamente después de su aprobación y no ahora un camino que tratándose de igualdad debe realizarse

un camino que promueva la corresponsabilidad y la redistribución de los trabajos productivos y reproductivos en las explotaciones agrarias y el mundo rural pero sobre todo debemos tener la mirada puesta en si la política que desarrollamos es feminista de forma genuina y está teniendo en cuenta

si está interviniendo sobre ellos o si estamos planteando los mecanismos adecuados para combatir

qué valoración hacemos de la aplicación de la misma qué impacto real tiene en la situación de las mujeres y si está sirviendo para los objetivos para los que nació esta herramienta

horizonte sino más bien el punto de partida para revertir la injusticia histórica una herramienta dinámica y sujeta a revisión y mejora tenemos que tener en cuenta que los análisis promovidos desde movimientos sociales campesinos por un lado insisten en que el estatuto a día de hoy aunque es una herramienta válida para el reconocimiento y visibilización del trabajo de las mujeres en el campo su texto puede incurrir en algunas contradicciones

dentro de las explotaciones agrarias que pueden perpetuar la invisibilización de mujeres agricultoras ganaderas productoras de alimentos etcétera por ejemplo

podría hacerse una lectura amplia si atendemos a la realidad de nuestro campo

por otro lado y estrechamente relacionado con la mejora de la vida de las mujeres en el medio rural es imprescindible abrir y extender un debate de fondo que se viene proponiendo de los movimientos sociales y campesinos hay que incorporar a las políticas

de agricultura hegemónico y cómo este afecta a las mujeres en el marco del estatuto y su desarrollo hay que incorporar visiones como el de la soberanía

son ejes fundamentales para avanzar en cambios de fondo y reales hacia la igualdad y la justicia en el medio rural en definitiva tal y como decíamos antes nosotras entendemos que este acuerdo es una gran oportunidad y abre las puertas para que en este parlamento

para intervenir sobre el medio rural seamos ambiciosas

hace tan solo un mes miles de mujeres en localidades pequeñas y rurales de toda euskadi se movilizaron para demandar cambios es una oportunidad y es una responsabilidad

que trabajan y viven en el medio rural y como ya ha dicho la señora

que basta ya de pilotos automáticos que basta ya de falta de recursos que necesitamos más políticas feministas reales en las formas y en el fondo y también en los recursos

hace referencia a la ley del estatuto de las mujeres agricultoras tando que se pone de manifiesto en la interpelación

el gobierno y las diputaciones no están cumpliendo con la ley dice la exposición de motivos de esta ley este estatuto toma los derechos de las mujeres agricultoras como punto de partida y concreta las obligaciones de las administraciones para garantizar su ejercicio efectivo

en que las administraciones no han empezado a asumir las obligaciones que esta ley les exige después de dos años y medio estamos en que en el propósito de ahí nos hemos quedado es urgente que actuemos si nos fijamos por ejemplo en la edad en los datos de edad y de sexo de los perceptores de ayudas directas y de desarrollo rural en el país vasco en el año dos mil dieciséis de los tres mil seiscientos expedientes de ayudas dos mil trescientos cincuenta y seis son de hombres para hombres

son para mujeres pero si nos fijamos por edades

el porcentaje de mujeres es el veinticuatro por ciento de verdad si fijamos entre cuarenta y sesenta y cinco el porcentaje de mujeres es el treinta y cinco da un dato muy importante y es que cada vez se incorporan menos mujeres a la actividad agraria no solo pasa con esta actividad pasa también con otros sectores que

y eso también tenemos que trasmitir las mujeres del campo en primer lugar

es bueno que no pasa nada por ser agricultora que es una actividad como otra cualquiera y que necesitamos también mujeres en el campo

su objetivo el de trabajar y propiciar que los derechos de las mujeres agricultoras su reconocimiento profesional su estimación social el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales sociales laborales y fiscales se

porque esta ley obedece a un mandato y recomendaciones de varias directivas europeas que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades de igualdad de trato

de una actividad autónoma en materia de seguridad social de empleo y de contratación compartimos los puntos que se recogen en la moción pero hemos querido poner en valor el trabajo de investigación realizado por hazi a raíz de la aprobación de esta ley

más precisa sobre la realidad actual de las agricultoras vascas identificar sus necesidades y cuál es el grado de participación en todos los ámbitos de la actividad agraria

concreto a la sociedad vasca que es la que realmente nos está aportando los datos reales estudios hay muchos pero concretamente

un informe de investigación con el que se pretende establecer un punto de partida que permita medir el impacto que la aplicación del estatuto va a tener

hay que incorporar sistemas de evaluación a toda la acción política y esta herramienta no tenemos otra nos parece un buen comienzo en este informe de investigación tiene bastantes datos y hay alguno que me ha gustado especialmente qué piden las agricultoras no qué pide el pp qué pide el grupo nacionalistas vascos

y en el que las administraciones deben de fijarse piden mejorar la imagen del mundo rural efectivamente eso va a contribuir a que más gente mire con cariño la actividad agraria y eso es muy importante

no son oponentes sino complementarios poner en valor las características únicas de este sector

motor del mundo rural transmisión de saberes de generación a generación y cómo no

del país generando riqueza también actividad económica

de la utilidad del sector agrario vasco no únicamente como símbolo de nuestro pasado sino como parte importante de nuestro futuro transmitir los valores rurales

menor soledad en todas las edades pero principalmente en las personas mayores más facilidad para encuentros intergeneracionales

tanto para la juventud y la infancia como para las personas más mayores valorar a las personas mayores como fuente de conocimiento son personas que tienen unos saberes que no se encuentran en los libros

tienen el saber de la experiencia y de un trabajo bien hecho

reducir la burocracia al poner en marcha una nueva explotación agraria los comienzos son muy complicados servicios como gaztenet ayudan pero no son suficientes

sobre edificabilidad para el sector agrario diferente trato para edificaciones necesarias para la actividad agraria y para el resto no se trata de hacer en el campo sino de crear estructuras que faciliten la labor agraria cuántas dificultades para hacer

una nave agrícola o ganadera o del sector primario preservar los usos agrarios del suelo antes de que no haya nada que preservar en la contratación ayudas a la contratación principalmente de mujeres ceses anticipados bajas laborales a pesar de que ya existe este tipo de ayudas parece que la forma de difundirlas no es la más adecuada ya que no llegan a las interesadas

de las diferentes opciones de contratación relacionadas con el sector en la comercialización poner en valor el producto local no solo por su localidad alimenticia que la tiene sino también por el papel de gestor del paisaje que desarrolla

aunque no tenga etiquetas de calidad oficiales establecer una red de mercados locales para productoras y productores locales

establecer nuevos horarios más acordes a las costumbres actuales crear páginas web para facilitar el encuentro entre los que producen y los que consumen en el sector servicios qué piden las mujeres agricultoras

tanto a nivel social como agrario los servicios médicos básicos

mejorar el transporte público espacios de reciclaje en todos los municipios rurales y qué piden a las administraciones

pelear por una ley para todo el espacio europeo ampliar los productos ecológicos que están recogidos

no recoger únicamente productos destinados a la alimentación también de ornamentación de construcción textil etcétera reconocer como enfermedad profesional

se debe cambiar la legislación básica de acorde con las necesidades reales del mercado y del sector productor

a las asociaciones a los sindicatos establecer nuevos horarios en asociaciones sindicales políticas o sociales

no sea un hándicap a la hora de tomar parte de ellas promover la participación de las mujeres

la enmienda que nosotros hemos hecho de adición a la moción que se ha presentado va en poner en valor estas cuestiones que son las peticiones que las agricultoras hacen
a las administraciones vascas muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

presidenta señorías en nuestra sociedad está

está prohibido jurídicamente legalmente pero sin embargo existe y por lo tanto es evidente que

medidas complementarias a las que se vienen tomando para que se pueda ir reduciendo hasta conseguir acabar con esa discriminación

porque a pesar de tener una amplia legislación

a pesar de tener directivas europeas leyes españolas leyes vascas el propio estatuto de la mujer agricultora es una ley a pesar de todo ello esa discriminación se sigue produciendo y cuando se va a los datos

la señora lópez de ocariz ha dado algunos datos es cierto que por ejemplo en la titularidad de las explotaciones agrarias la desproporción es enorme y pudiera parecer que esto viene del pasado que es una herencia del pasado

el acceso de los jóvenes a las titularidades de las explotaciones agrarias también va guardando esa misma proporción de discriminación

acceden a esa titularidad por lo tanto es un problema del pasado que se arrastra pero es un problema también del presente y es un problema del futuro

adecuados yo quiero celebrar especialmente hoy este consenso este acuerdo por muchas razones

en que concreta cosas y resuelve cosas y pone tareas y se compromete y es más autoexigente

debate para no concluir nada sino simplemente

las posiciones de cada cual ante los asuntos que se tratan hoy vamos a un escenario mucho más pragmático hoy hay un planteamiento político de consenso total en el que se plantean objetivos se plantean recursos económicos

sistemas de seguimiento de control de evaluación se plantean plazos es decir hoy hay en este parlamento una disposición política útil hacia la sociedad en este caso hacia ese sector concreto de la mujer agricultora y por lo tanto

de celebración yo creo que es bueno que en esta cámara en la que la mayoría absoluta con amplia holgura es de mujeres

entre otras razones porque hace unas semanas tuvimos la oportunidad la mesa de este parlamento de estar

en ese encuentro en la onu de mujeres

rurales que planteaban el empoderamiento y que propició no solamente que nos incorporáramos a los trabajos generales

un montón de encuentros con asociaciones internacionales que se dedican a las políticas de igualdad y también con muchos países que allí estaban trabajando y una de las cosas que se destacaba mucho cuando se hablaba de la participación que en esto del protocolo de hablar en esos encuentros

proporción de hombres y mujeres en vuestro parlamento muchos países incluso europeos se quedaban

cuando en algunos otros países teniendo participaciones del quince el veinte el veinticinco por ciento

avances enormes y además en sociedades con democracias mucho más longevas que la que pueda ser la nuestra por lo tanto euskadi es

en estas políticas de igualdad en estas políticas efectivas de igualdad y como hay condiciones para seguir avanzando yo creo que es muy interesante y muy oportuno que hoy aquí demos un paso más que a las leyes que ya generan el marco en el cual después hay que trabajar se le dote de esas medidas de eso medios de esos recursos que puedan hacer que estas políticas

lleguen a buen puerto y se pueda alcanzar ese plano de igualdad

en este sector como en cualquier otro sector de la sociedad por lo tanto celebrar

celebrar que vayamos a la concreción que este parlamento

que tendrá después que responder de ellos que este parlamento pide al gobierno acciones concretas que tendrá que responder de ellos porque yo creo que ese es el objetivo fundamental la razón de ser de la política que

esta capacidad de tomar decisiones en decisiones prácticas y en solución de problemas muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

desde el punto de vista económico social familiar educacional y de transmisoras de conocimientos una dura tarea histórica que desgraciadamente siempre se ha llevado en la sombra se han responsabilizado de las tareas domésticas además de todas las labores que se llevan a cabo en las explotaciones agrarias desde las tareas del campo la transformación y la comercialización la mujer está presente en todo el proceso y no se reconoce muchas de ellas nunca han estado inscritas en la seguridad social hace que la jubilación sea todavía la discriminación más profunda y no podemos olvidar que han sido ellas las que con su lucha en muchas ocasiones han contagiado a diferentes generaciones para que se hagan cargo de las explotaciones para que sigan adelante para que sigan innovando y mejorando

este estatuto que hoy nos trae aquí resulta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en él se exige entre otras cuestiones

los órganos directivos sean igualitarios así a través de acciones positivas permite dotar de mejores puntuaciones a las explotaciones lideradas por mujeres

y se aprobó por unanimidad porque se trata de una buena norma que mejora la situación de las trabajadoras porque todos y todas entendemos que es una realidad que hay que corregir

y en eso estamos en subsanar errores en hacer realidad el estatuto

las cifras anuncian un ligero ascenso el treinta y ocho coma dos por ciento de las dueñas de explotaciones agrícolas son mujeres y las jefas de explotación son un treinta y cinco coma cinco por ciento

estos datos no son suficientes obviamente tenemos que seguir aumentando el número de mujeres titulares de explotaciones porque esa es la prioridad de esta ley promover su acceso debemos continuar fomentando la contratación de mujeres en el sector favorecer la incorporación de las más jóvenes y garantizar su presencia en los órganos de decisión

obviamente compartimos que el desarrollo de esta ley va con retraso incluso la consejera tapia lo reconoció en esta misma cámara cuando fue interpelada por este asunto

para el departamento que ella dirige reconoció que se ha tardado sí pero no han estado parados han estado recabando los datos necesarios de una realidad muy heterogénea

son muchas mujeres de diferentes lugares y en diferentes circunstancias y con diferentes trabajos dentro del medio rural y es necesario tener esa fotografía de la realidad concreta que existe

el impacto que la aplicación del estatuto va a tener en la vida de las agricultoras como bien explicó la señora tapia se ha puesto en marcha la comisión de seguimiento que establece el estatuto

diferentes líneas de actuación y se han creado cuatro grupos de trabajo el primero se encargará de la actualización y evaluación del registro de titularidad compartida de las explotaciones el segundo impulsará la visibilización del estatuto y garantizará la presencia equilibrada de las mujeres

un tercer grupo evaluará las necesidades formativas de las mujeres que trabajan en explotaciones agrarias y el último revisará que la normativa vigente se ajuste a la perspectiva de género

del necesario para todo ello y que se podría ampliar incluso si fuera preciso decía usted señora lopez

a la onu basado en las medidas del estatuto que hoy debatimos efectivamente y eso le enfada qué le enfada no le enfadará más que no haya sido usted la que lo haya presentado

porque eleve a nivel mundial un estatuto referente para nosotras permíteme pero es que su enfado no lo entiendo

orgullosos de que haya sido nuestra europarlamentaria izaskun bilbao la que haya llevado ese estatuto

y para nuestro grupo es muy importante que se cumpla el estatuto por eso presentamos junto a los socialistas vascos una enmienda que además iba en sintonía con la del grupo

entre todos los grupos una iniciativa que ahonda en la necesidad de desarrollar el estatuto que es por lo que estamos aquí y estamos de acuerdo

la enmienda en la que solicitamos al gobierno vasco que presente un calendario con los objetivos para ejecutar el estatuto y un informe anual sobre la evaluación del impacto de género de dicho estatuto también pedimos que se dote económicamente así como información y formación a los agentes del sector para que se adecuen a las necesidades legales por supuesto también que se garantice la participación de diferentes agentes y fundamentalmente la de mujeres en el desarrollo del estatuto por otro lado en esta enmienda

iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen de la actividad que desarrollan las mujeres en este sector y también incluimos un último punto que para nuestro grupo es fundamental para este estatuto para que pueda despegar y es su divulgación además de

las ayudas y el apoyo administrativo del que disponen las mujeres agricultoras por tanto nos alegramos del acuerdo alcanzado para seguir luchando contra la discriminación
porque hacer frente a ella es de justicia social besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

señora molina le aseguro que todos mis males ninguno de todos ellos está dentro de esta cámara están todos fuera y bastante lejos

agradecer de nuevo a todos los grupos la capacidad de trabajo la capacidad de consenso y también

y hoy he oído al compañero que decía jornada de celebración efectivamente

y que sean ellas las protagonistas que ya está bien entonces yo desde euskal herria bildu reclamamos tres cosas así muy concretas

desde luego abierto a cambios claro pero efectivo reclamamos un estatuto con presupuesto a futuro

nos conformamos y ahora sí que acabo pero voy a acabar proponiéndoles un reto

coja tres explotaciones coja tres granjas tres labranzas tres caseríos lo que se quiera con mujeres al mando y vayamos a visitarles y veremos que la situación es real que la situación grave de la que estamos hablando hoy aquí es cierta

y en cierta manera de poder representarlas eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe

la oportunidad que tenemos con esta iniciativa para iniciar el camino uno de tantos que

desigualdades en todos aquellos espacios que vivimos transitamos y habitamos

política sobre todo a una que este camino y todos deben realizarse desde una perspectiva sí o sí

y la redistribución de los trabajos productivos y reproductivos y la necesidad de

insistir en que es un buen acuerdo lógicamente que tiene razón que la realidad es esa es la que hay y que este estatuto
no representa a una persona obviamente representa a todas las mujeres a mí la primera porque soy mujer y soy rural o sea que me felicito por ello también eskerrik asko